un fantasma recorre euskadi un fantasma de millónes de euros excedentarios un fantasma

con muchos nombres pero pocas caras black rock amber capital los fondos inmobiliarios elandis

desregulaciones pasadas y este fantasma busca una sola cosa rentabilidades a corto plazo comprar barato

planean en círculos esperando el momento perfecto para abalanzarse sobre su presa viviendas en los cascos históricos

en las ciudades concesiones de infraestructuras hoteles viviendas protegidas que vuelven al mercado libre y también empresas rentables que son estratégicas

a esto es a lo que se enfrentan hoy las ciudades pueblos empresas y ciudadanos de medio mundo producto de un proceso desregulador de décadas y de sucesivas crisis

a escala mundial ha pasado de cincuenta y seis billones de dólares en mil novecientos noventa

en el dos mil diez en dos mil diecisiete el conjunto

de la historia hasta la fecha diecisiete coma ochenta y ocho billones de dólares al año mientras que las transacciones en divisas por ejemplo

al día así la banca en la sombra como se le suele denominar a la que pertenecen los trágicamente famosos fondos buitre

billones de dólares en todo el mundo casi la mitad

financieros a nivel mundial es decir que la mayor parte del dinero que circula a nivel financiero ahora mismo en el planeta es especulativo las transacciones han aumentado en la misma proporción así como los productos financieros y su complejidad

futuras de casi cualquier actividad de servicio activos

activos intangibles estamos en una fase del capitalismo financiarizado en el que los fondos que gestionan las carteras de las mayores fortunas y los bancos lejos de crear nueva industria se limitan a

descapitalizando las empresas para maximizar los flujos de caja a corto plazo esta es

innegable pero no inamovible ustedes los grupos que sostienen al gobierno se han empeñado en hacer creer a la ciudadanía que estos procesos son naturales e inexorables algo así como un fenómeno

pero simplemente no es así este fenómeno que he descrito en la primera parte de mi intervención no es sino el resultado de unas políticas que ustedes allí donde han tenido

se han dedicado a alentar e instigar y que ahora aceptan como verdad absoluta e inamovible la economista

quien ha sido recientemente contratada por sus compañeros de la diputación foral de bizkaia nos advierte

que se le supone al capital riesgo estadounidense está sobredimensionado las grandes operaciones de inversión de capital riesgo se hacen en empresas que se encuentran a menos del mercado frecuentemente en transacciones con un fuerte componente especulativo como las fusiones adquisiciones y operaciones apalancadas que dejan a las empresas sobreendeudadas y con estructuras operativas escuálidas la finalidad de estas operaciones es conseguir un salto en el valor de la cotización bursátil no aportar nuevos fondos para el desarrollo de la innovación y luego

nosotros y nosotras desde elkarrekin podemos ezker anitza creemos que lo que ha sido creado por la política debe ser atajado también de forma política

que buena parte de este desaguisado difícilmente puede ser calificado de otra forma tiene que resolverse en otras instancias principalmente a escala europea pero aquí en la casa de la soberanía vasca nos corresponde hacer

dentro de nuestro marco competencial pero con absoluta firmeza para defender los intereses comunes de la ciudadanía y del país en este sentido y a partir del terrible precedente que nuestro o que nuestra parecer sienta

con euskaltel pero también y de igual gravedad lo que ocurrió con la liquidación de las carteras industriales de kutxabank nuestro grupo a raíz de estas circunstancias presenta esta iniciativa destinada a explorar de forma decidida mecanismos

de cualquier naturaleza en empresas que por su relevancia en el tejido productivo en el empleo o por pertenecer a un sector de futuro sean estratégicas para el país

por una parte y teniendo en cuenta la situación de absoluta excepcionalidad la pandemia pero que desconocemos cuándo habrá de terminar creemos que es necesario un mecanismo regulatorio que permita intervenir en el caso de que empresas estratégicas corran el riesgo de ser adquiridas por este tipo de agentes o buitres es fundamental que esta cámara exprese su voluntad inequívoca de estudiar

de este objetivo explorando los mecanismos que sean necesarios para evitar

en sectores o empresas determinantes para el futuro de este país así

que ha creado el gobierno de españa a partir del régimen de suspensión de inversiones extranjeras realizadas por inversores residentes en países fuera de la unión europea y de la asociación europea de libre comercio

y con toda la prudencia que requiera una regulación que somos conscientes es delicada y por otra parte y esta quizás sea incluso más relevante euskadi necesita

de innovación y desarrollo tecnológico mecanismos a la altura de los retos que tenemos por delante no habrá transición ecológica energética sin capacidad de inversión pública no habrá cambio de la matriz productiva

pública y sobre todo no habrá una sociedad que no deje a nadie atrás a la vez que sigue teniendo su lugar en el mundo sin capacidad de inversión pública por eso a la reforma fiscal que acabe con el butogobierno para unos pocos

de educación y de todos los ámbitos de la administración le tiene que acompañar

una banca pública ha quedado en evidencia que los mecanismos que ha desplegado el gobierno vasco en el ámbito de la inversión los instrumentos y fondos de capital han

no solo por las cifras que resultan ante semejante escenario irrisorias sino por la sangrante destrucción de empleo que vivimos necesitamos una intervención de política industrial decidida

instrumento que puede contar para capitalizar empresas garantizar su arraigo y que se rijan al menos en parte también por el interés común y el interés de país

se ha apostado a lo largo de los últimos años por los fondos de capital riesgo o inversión

el modelo estadounidense pero carecemos de un tejido mínimamente potente de sociedades de capital riesgo que lo único que hacen es reciclar excedentes

pero no tienen capacidad de generar nuevos fondos para inversión en euskadi hay apenas unos pocos fondos que como talde abe ese fondo que solo ha hecho una inversión en león desde que se creó en dos mil diecinueve

con cifras que como ya decía nos parecen irrisorias trescientos millónes de euros un repaso a la rentabilidad de las inversiones realizadas por estas entidades demuestra un historial

kutxabank se ha retirado una a una de todas las inversiones estratégicas del país

entre otras la cartera industrial de kutxabank se ha reducido a la mitad en los

y la inversión del banco en esas empresas se ha reducido en cerca de un tercio kutxabank ha reducido su cartera de participaciones industriales a menos

cuatro veces menos que en dos mil doce está lejos de las competencias del gobierno vasco

pero este desincentivo a la cartera industrial es perverso porque destruye el tejido

puede dar mucha rentabilidad a la banca en la situación actual no vale tirar de viejas fórmulas o de repetir como hacen aquí habitualmente

que es un entorno muy competitivo las tendencias de los sectores

toca liderar e intervenir en el sector privado lamentablemente sabemos que no será así porque no solo o no es solamente que ustedes se nieguen a intervenir en lo privado

al sector privado a las grandes consultoras del partido o internacionales

esas lógicas ya nadie en el consenso mundial niega esta necesidad

liderar la recuperación y también nuevos arreglos fiscales por eso hoy volvemos a traer una iniciativa

volvemos a instar al gobierno vasco a trabajar por ese objetivo ampliar la capacidad del instituto vasco de finanzas y convertirlo en una verdadera herramienta una a la altura de las circunstancias
una banca pública eskerrik asko eskerrik asko

antzerki lana orain uste dut pirandellorena dela seis personajes en busca de

enpresa bat dago en busca de comprador empresa vasca en busca de comprador vasco eta ezin eta ezin eta ezin eta ezin dugu eta ze zailtasunak

kutxabank ha desarrollado en los últimos años en este país el mayor proceso de desinversión industrial de la historia de nuestro pueblo

y se ha estado vendiendo en kutxabank las joyas de la abuela para poder comprar la comida y todo el mundo sabe que eso no tiene recorrido que no tiene

en un periodo de diez años no de un día para otro de diez años desde que se establecieron las regulaciones europeas que marcaban limitaciones

los bancos se ha sido incapaz de articular un sistema que evitara que ese proceso de desinversión

y no se ha hecho y no se ha creado un holding y no se ha creado un sistema activo por parte de las fundaciones para adquirir

de ese capital o de esas acciones y tampoco el gobierno vasco ha estado ahí con un fondo salvo operaciones puntuales más cosméticas la de caf y la de kaiku que al final no

el arraigo porque lo que hacen es unas acciones que están en manos de capital vasco quitarle el marrón de imagen a kutxabank y pasárselas a una institución pública no a finkatuz que no existe sino al instituto

gracias presidenta vicelehendakari consejeras señorías buenos días miren el arraigo de las empresas estratégicas en euskadi no es un debate ni novedoso ni lejano en el tiempo en este parlamento

es algo por lo que se lleva trabajando mucho tiempo tanto desde el ámbito político como desde la gestión institucional tanto en ayuntamientos como en diputaciones forales

el arraigo empresarial y evitar la deslocalización de las empresas establecidas en euskadi no requiere enfocar el asunto en una intervención puramente económica y financiera

más complejo multisectorial y global vivimos en un mundo globalizado en el que las inversiones cruzadas transfronterizas los cambios de localización de tareas y propiedad y la utilización de tecnologías de la información hacen que la competitividad empresarial adquiera también una dimensión global las empresas

con mercados abiertos logística y tecnologías en constante proceso de innovación y una competencia cada vez más intensa por eso en ese contexto la empresa debe ser capaz de satisfacer las necesidades de sus clientes

proporcionándoles también bienes y servicios más interesantes y para que la lucha contra la deslocalización tenga efectos positivos es necesario llevar a cabo nuevas estrategias empresariales que doten al producto de un valor añadido estrategias basadas en la calidad

intensidad tecnológica y sin duda utilizar la política financiera a favor del empleo la recuperación económica el arraigo empresarial la innovación

y de ahí que el compromiso que expresaba el consejero de hacienda cuando nos explicaba las líneas estratégicas

haciendo alusión al proyecto de ley señalado en el calendario legislativo para regular de una manera definitiva el instituto vasco de finanzas con el fin de poder disponer de una normativa autónoma que promueva el surgimiento de una entidad pública de financiación al servicio de políticas públicas y participación empresarial en sinergia con los instrumentos industriales empresariales y corporativos es algo más

un compromiso y en la pasada legislatura el gobierno vasco por un acuerdo de esta cámara inició un camino

en la enmienda transaccional que he visto que nos ha llegado ahora tanto para la administración

con la adquisición de participaciones accionariales que buscaban el arraigo de empresas estratégicas en euskadi para mantener y desarrollar el tejido productivo vasco fuimos en ese caso una administración pionera la pandemia trastocó la planificación prevista en dos mil veinte pero no solo no se ha renunciado a seguir profundizando en esa estrategia sino que

al instituto vasco de finanzas para la creación de una sociedad con un capital de ciento sesenta millónes que gestionará

con una ampliación hasta trescientos millónes de euros destinado a la adquisición y gestión de participaciones financieras en grandes empresas de euskadi

y así este instituto vasco de finanzas podrá poner a disposición de la nueva sociedad pública acciones participaciones en el capital de sociedades mercantiles

obligaciones créditos y cualquier otro derecho similar de su titularidad atendiendo a criterios de inversión y a principios de actuación previstos en sus estatutos

y que son herramientas muy adecuadas para los fines que al menos ustedes plantean en su iniciativa y ustedes plantean que se coordine con el gobierno de españa en la aplicación del real decreto ley ocho barra dos mil veinte de diecisiete de marzo

de diecisiete de noviembre para identificar las empresas sobre las que se aplica el régimen de suspensión de inversiones extranjeras en españa cuando en realidad

como la de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial al sector

con vigencia por cierto hasta el treinta de junio lo que pretenden es incrementar y prorrogar los controles administrativos previos a determinadas inversiones extranjeras en empresas españolas con el fin de proteger sectores estratégicos de la economía y evitar que

aprovechen la situación de vulnerabilidad para adquirir empresas españolas las inversiones extranjeras sujetas a ese mecanismo de control administrativo que se lleven a cabo sin la preceptiva autorización carecerán de validez

el importe de la inversión realizada la inversión extranjera en empresas españolas es clave para el desarrollo en particular en los sectores de mayor innovación y de mayor valor añadido y una parte significativa de esa inversión proviene de fuera de la unión europea en particular de estados unidos y tras el brexit también del reino unido

bruselas pide más poderes para contener la llegada de empresas subvencionadas hoy lo que hace un año era un proyecto de trabajo hoy se convierte en un reglamento fundamentalmente que articula una herramienta para blindar las infraestructuras esenciales

público en sus países de origen un semáforo que se levanta pensando en china que durante años ha ido desplegando una red de inversiones que le ha permitido hacerse con empresas de neumáticos aerolíneas aeropuertos

e incluso equipos de fútbol pero también en el punto de mira está reino unido y la desconfianza

podría abrir la mano a ayudas multimillónarias para que las firmas británicas puedan competir en mejores condiciones

consensuar por los veintisiete y también por la eurocámara este reglamento

muy importante en lo que el señor soto venía o quería plantearnos

de ahí que analizada su propuesta señor soto en sus tres aspectos la iniciativa original los socialistas hayamos presentado una enmienda conjuntamente con nacionalistas vascos en la que instamos al gobierno a trabajar en tres ámbitos y con las siguientes herramientas

y en colaboración con los diversos agentes económicos se determinen identifiquen y prioricen los sectores y empresas tractoras de los mismos

se puedan tomar participaciones para garantizar ese arraigo empresarial por otra parte defendemos o pretendemos mejor dicho que el gobierno vasco cree un sistema de competitividad un ecosistema de competitividad que refuerce

ciencia tecnología e investigación en colaboración con el sector privado mediante ayudas de forma que se pueda responder a las necesidades de nuestras empresas

en ese ecosistema de competitividad y en tercer lugar y en el marco de ese ecosistema de competitividad se hace más necesaria que nunca la formación de profesionales

siendo un elemento que los socialistas vascos consideramos determinante para el arraigo de las empresas en euskadi los socialistas vascos pensamos que elkarrekin podemos izquierda unida en su iniciativa

exclusivamente en la existencia de un mecanismo legal que evite la entrada de capital extranjero en nuestras empresas y nosotros creemos que esa no es la vía del arraigo primero porque la actividad empresarial en euskadi y en el mundo se sitúa en un entorno cada vez

un entorno en el que se suceden las operaciones corporativas los cambios de estructura accionarial y esas operaciones entre empresas privadas por sus propias características nacen de la voluntad de las partes y se contextualizan en el ámbito privado de la gestión de las compañías por eso compartimos con el gobierno vasco la necesidad de crear

económico tecnológico y social vasco que permita ahondar en el arraigo de las compañías vascas y en las empresas tractoras para que las pymes y las micropymes que caracterizan nuestro tejido industrial se vean beneficiadas

por su crecimiento en el ecosistema económico tecnológico y social y por su consolidación no es una tarea menor para esa reactivación económica que tiene que darse
en breve y con la que estamos desde luego comprometidos los socialistas vascos muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea

a las empresas el ser vasco o vasca empresa vasca

haya crecido en euskadi sector emprendedor que siempre

plan pie plan interinstitucional de emprendimiento dos mil veinticuatro

un plan de país en colaboración público privado e interinstitucional la familia la familia de las empresas sería el sector industrial

y dentro de las familias las que normalmente en euskadi han tirado del carro son las amas y si hablamos de las amas en el mundo de las empresas serían las empresas tractoras

generando un valor añadido a euskadi aquellas que llevan el nombre de nuestro país

a mercados internacionales y son marca de identidad del buen hacer de miles y miles de nuestras empresas y profesionales empresas que queremos que se mantengan en euskadi y para ello proponemos nuestro primer punto de la enmienda que como ya lo ha

pero hay que decir que este gobierno lo tiene presente desde el inicio y así lo ha recogido en su programa de gobierno compromiso catorce iniciativa ocho

de proyectos industriales estratégicos que favorezcan el arraigo en euskadi de la actividad industrial y atracción del nuevo proyecto empresarial e iniciativa once del mismo compromiso

garantizar el arraigo de las empresas tractoras vascas y su efecto dinamizador sobre nuestra economía

euros ampliables hasta los trescientos millónes durante la legislatura y cuyo objetivo social es adquisición enajenación y gestión de participaciones financieras a largo plazo

un carácter tractor las infraestructuras diríamos que son aquellas tanto público como privadas que nos hacen la convivencia más fácil y confortable que crean un entorno sostenible que nos hacen el día a día más sencillo aquellas que nos permiten llegar a distintos lugares de este planeta y nos hacen disfrutar de ello

momentos de mayor necesidad cuando hablamos de las infraestructuras para las empresas nos referimos al ecosistema donde nacen se ubican crecen

el talento yo hablaba al principio de la opción de trabajar en el sector público o privado y esto solo se consigue si existen ambas opciones

para ello necesitamos estar formados necesitamos estar preparados para poder afrontar esas nuevas situaciones que nos llegarán esas situaciones que nos exigirán estar capacitados y capacitadas para hacer frente a cualquier adversidad o poder reaccionar ante unas nuevas circunstancias

y de futuro y a esta cuestión hace referencia nuestro tercer punto

y seguir trabajando en crecer el ecosistema adecuado para la competitividad de las empresas de modo que garantice su arraigo en euskadi honek guztiak

gracias señora presidenta desde vox consideramos que es necesario para la economía nacional mantener el arraigo de las empresas sobre todo de las estratégicas es evidente que sí pero el camino para hacerlo que nos propone podemos nos llevaría a un desierto

el primer punto de la moción es simple y llanamente un disparate cuyo único fin se reduce empresas privadas y hacerlas públicas un planteamiento común en todas sus políticas hace unas semanas tratábamos en este pleno cómo una empresa estratégica ha sido adquirida por fondos norteamericanos euskaltel la razón principal por la que el gobierno vasco dio el beneplácito a esta operación

necesitaba hacer caja y kutxabank priorizó sus cuentas al interés general de arraigo de una empresa pero hay algo más

la mezcla de política y la banca suelen dar siempre el mismo resultado corrupción sin paliativos proyectos megalómanos financiados además con dinero público que terminan en la quiebra y todo ello dirigido por estómagos agradecidos en los consejos de administración por cuota de cada partido que no saben nada de banca en definitiva corrupción y pobreza veinte cajas de ahorros han afrontado juicios por corrupción no han sido casos aislados

de varias bancas públicas afrontan juicios por corrupción y administración desleal subidas de sueldo en plena crisis operaciones de dudoso riesgo favoreciendo siempre a empresarios amigos

y podríamos seguir porque la lista es interminable la fórmula para que las empresas estratégicas mantengan el arraigo en españa es muchísimo más sencilla que sus beneficios

y no a llenar las arcas gubernativas a través de los impuestos que les dejen trabajar sin injerencias externas que el estado sea un facilitador y no un obstáculo

propuesta que hoy nos trae el señor soto pretende evitar que se produzcan en el futuro situaciones como la de la venta de euskaltel a másmóvil es evidente de ahí

es por tanto una propuesta que yo llamaría una propuesta retrovisor

mirando hacia atrás para intentar evitar situaciones que ya no tienen remedio bueno hay una cosa que me gusta mucho de la propuesta y es que

una cierta un cierto fondo de apoyo a las empresas y eso creo que es bueno para la economía vasca para las familias vascas y para el empleo otra cosa es que discutamos o no estemos de acuerdo exactamente en cómo se debe de apoyar a esas empresas

el debate acerca de este asunto pero sí creo que debemos recordar que en nuestra opinión

en las operaciones que se produzcan entre empresas privadas como es el caso

creemos que el gobierno vasco no tiene ni que favorecerlas ni tampoco que evitarlas o ponerles inconvenientes independientemente de la historia que

pero efectivamente entiendo que el fondo de la iniciativa va más allá y pretende evitar que ciertas participaciones en empresas públicas privadas consideradas estratégicas empresas públicas consideradas estratégicas perdón sean vendidas y controladas por otro tipo de intereses bueno eso no ocurrirá en ningún caso

que puede ser el gobierno vasco no autoriza o incluso el parlamento como creo aquí en el caso de euskaltel no autoriza esa venta por lo tanto no hace falta entiendo yo

y si se aprueba será porque hay entiendo yo buenas razones para ello así que

poca utilidad nos gustaría que en vez de ser una iniciativa como decía antes espejo retrovisor

pero bueno nos parece que conviene que entremos a discutir las propuestas que hace el señor soto porque nos propone tres mecanismos un tanto heterogéneos entre sí que aunque

son tres ideas que en realidad no están en la raíz del problema

la creación de un banco público vasco y cuando nos preguntamos por qué y para qué

lo pone el señor soto dice para que pueda conceder créditos y tomar participaciones de empresas industriales

bueno nosotros en principio pensamos que la creación de un banco público vasco no tiene ningún sentido

estamos en un proceso paulatino de centralización y de concentración bancaria en europa y esta idea va en la dirección justamente contraria es decir el propio banco de españa

por ejemplo en política monetaria respecto al banco europeo y por lo tanto

distinto en segundo lugar porque

que declara la iniciativa ya tenemos herramientas en el país vasco tenemos efectivamente finkatu y tenemos el propio

y no entendemos muy bien por qué si ya hace esas funciones y además lo tiene así expresamente puesto

esto que el señor soto dice es decir conceder créditos y tomar participaciones de empresas industriales por lo tanto

de finkatu el otro instrumento que en euskadi tenemos para este tema trescientos millónes parece que hay disponibles para este fin y efectivamente todavía no ha empezado a funcionar pero esperamos que empiece a funcionar

no entendemos tampoco ninguna necesidad de crear otro mecanismo al respecto en la propuesta que han firmado en la transacción que han firmado proponen ustedes ampliar esta dotación bueno puede ser puede ser que sea insuficiente pero hasta cuánto y por qué

y si esto no se ha gastado todavía por qué ampliarlo y por qué no presentaron ustedes una

ahora ya ese tipo de cosas son un poco tarde en segundo lugar proponen ustedes que el gobierno vasco establezca mecanismos de coordinación con el gobierno de españa

de inversiones extranjeras ese régimen tiene su sentido en una época como la pandemia que es proteger efectivamente a las empresas de opa hostiles

señor soto es que lo pida usted cuando está su partido en el gobierno de españa

que inste al gobierno de españa hágalo usted directamente que se supone que puede hacerlo está usted en el consejo de ministros

al respecto o es que quizá esta propuesta en madrid no sería

este recoveco que no termino de entender y me pasa igual con bildu son socios del gobierno de españa pues efectivamente lo que pueden hacer es proponerles a sus socios

y por otra parte lo que me ha preocupado al leer su propuesta señor soto es

que el gobierno vasco tenga esa información es decir para qué quiere usted

con qué objetivo qué piensa usted que se puede hacer con esa información

de intento de compra lo que significa simplemente es que se trata de una empresa interesante y competitiva

se puedan producir situaciones no deseadas por nadie bien pues ya está no hace falta que sepamos todos cuáles son esos intentos no sé no entiendo

es decir esta propuesta también consideramos que no tiene ningún sentido y la tercera parte de su moción propone medidas para evitar entradas de capital especulativo en las empresas estratégicas vascas supongo que usted le llama a esto fondo de capital riesgo ya sabemos que lo consideran agentes del mal

judeomasónica y neoliberal que persigue la destrucción de la clase obrera o algo así en fin cada uno es libre de sugerencias a mí las suyas me parecen un poco antiguas

libertad lo que sí que le puedo decir es que los instrumentos de capital riesgo

que está regulado por ley en el país vasco en españa en europa y en el resto del mundo si esa regulación no nos parece suficiente

propongan ustedes modificaciones legislativas al respecto pero mientras que esos fondos cumplan con la legalidad

permitiendo es una libertad fundamental que es la libertad de inversión la libertad de capitales por otra parte si esta

y el gobierno vasco cometiese el error de evitar la entrada de fondos de capital riesgo en aquellas empresas que considerase

de un instrumento financiero de primer orden que en ciertas situaciones puede incluso ser vital para el desarrollo o

es decir las empresas recurren a capitales que funcionan

para sus diferentes necesidades en tesorería y efectivamente el mercado tiene créditos la banca puede conceder créditos a corto plazo a medio plazo y a largo plazo

para solventar ciertas situaciones que pueden ser necesarias es decir en ningún caso nadie obliga a invertir o a ninguna situación

en absoluto esta es la razón señor soto porque ninguna de las tres

negativamente a su propuesta no nos parecen propuestas que sean sensatas ni adecuadas ni buenas para euskadi

entendemos que tiene un objetivo solo que es parar la propuesta inicial y para ello propone hacer nada hacer nada nuevo tomar participaciones con finkatuz en el caso de que cumplan los requisitos es decir lo que ya está previsto

crear un ecosistema de competitividad en colaboración con el sector privado cosa que nos parece muy interesante

en su propuesta no sustancian nada en concreto con lo cual la propuesta se queda en nada y continuar con la formación universitaria y formación profesional

se está haciendo evidentemente estamos continuando por lo tanto no hay ninguna propuesta concreta y entiendo que si el objetivo es parar la iniciativa eso se consiga

se preguntaba que para qué una banca pública

un banco de desarrollo del estado de la república federal de alemania kfw que dispone en su cartera

millónes en participaciones en empresas industriales alemanas

para capitalizar con dinero de un banco público empresas estratégicas del país eso es lo que hacía

de los años lo que ha hecho es perder capitalización en empresas estratégicas de una manera constante y permanente es decir

a mil millónes en fin eso cuando luego se habla

mencionado la representante del partido socialista de euskadi cuando se habla de eso y luego a su vez cuando hemos dispuesto

kutxabank o las cajas de ahorros en su día que luego hayamos pasado a diluir su

es decir que apoyemos la regulación y reglamentación

extranjeros en europa como se hace a nivel europeo y como se ha hecho

haciendo pero luego a su vez los instrumentos de capitalización propios para el arraigo de la participación pública en empresas se vaya diluyendo me parece una contradicción absoluta por otro lado se liga lo que es el instituto vasco

un fondo que a la vista de lo que he mencionado en mi primera intervención respecto al nivel

de capitalización que disponen los fondos de inversión extranjeros que son miles

esa realidad con básicamente trescientos millónes difícil

difícil que con trescientos millónes logremos un arraigo fruto

con el instituto de finanzas creemos que esa no es la vía y que no va a resolver nada va a ser básicamente

al aumento de la cantidad de dinero en este fondo que luego además

en su integridad es decir se elevan las cantidades que se integran en este fondo pero luego alguna

se va a utilizar el dinero realmente en entrar en la participación de empresas estratégicas de este país no sucede luego por otro lado se habla del ecosistema que he oído hablar de la cuestión del ecosistema a la consejera y a los partidos que

siempre generando la pista de aterrizaje para que los fondos de inversión que se supone

que no entren o que entren en su justa medida siempre generando

y desarrollo no sé desde luego con qué universidad pública porque la universidad pública vasca

infradotada y luego por otro lado lo único que se pone encima de la mesa o en la palestra son proyectos para inversiones privadas que en nuestra opinión lo único que vienen a reflejar es que no existe un modelo público de inversión

del interés del gobierno vasco ser quien lidera los proyectos de inversión que las empresas debiesen de hacer entiendo que las empresas tienen plena autonomía para decidir

del interés del gobierno vasco generar inversiones de interés general ligadas con las empresas privadas y que sea desde el sector público desde donde se marque la ruta que habría que

que la realidad de la pérdida de inversión de kutxabank y de las cajas de ahorros y la nula intención por parte del gobierno vasco y los partidos que sostienen al mismo

el gobierno vasco no disponga de una herramienta fundamental para el arraigo

de las mismas creemos que no que con instrumentos como finkatuz no va a ser suficiente

si no se aborda desde el instituto su reconversión en una banca pública va a ser muy complicado eskerrik asko eskerrik asko

ejemplos treinta y seis millónes costaban los terrenos de la naval

la mejor oferta treinta y seis millónes una empresa pública o público privada que hubiera puesto treinta y seis millónes tendría encima de la mesa hoy la garantía de una actividad industrial en esos terrenos euskaltel

ese cinco por ciento más la aportación de kutxabank que tenía el veinte por ciento

ciento cincuenta millónes capacidad de haber vetado la opa euskaltel seguirá siendo una empresa bajo control vasco y arraigo vasco itp unocero unoquinientos millónes están en juego tampoco se plantea que se compre el cien por ciento por parte pública pero va a haber

de cien millónes por eso necesitamos recursos y recursos

que no es la instauración del comunismo sino es el sostenimiento y el arraigo al país de empresas que son importantes porque son importantes las telecomunicaciones porque es importante el sector naval y es importante la margen izquierda y porque es importante el sector aeronáutico que además está sumido en un proceso de reestructuración fundamental inermes ante todo este proceso mientras los fondos tienen capacidad es que nos ha levantado euskaltel zegona que eran dos colegas con un despacho eso sí muy bien relacionados pero es que no tenemos capacidad de hacer frente luego ya otros fondos los de másmóvil y demás juegan en otra liga pero es que mira ni a los pequeños ni a los medianos tenemos capacidad de hacer frente el fondo finkatuz bueno

al señor azpiazu hablar del fondo finkatuz me viene a la cabeza el cuento de pedro y el fondo porque algún día vendrá

porque al final no le crees algún día llegará el fondo y habrá fondo espero confío que haya fondo

en dos mil diecisiete en dos mil dieciocho en dos mil diecinueve

ha vuelto a ser anunciado y yo no tengo nada en contra de este fondo hemos sido impulsores llegamos a un acuerdo con el gobierno dijimos este es el camino

aquí nos tienen no para meter palos en las ruedas sino para animar y también condicionar intentar que ese fondo se active en una dirección si ese acuerdo ya lo tenemos por eso no vamos a firmar un acuerdo con el gobierno el acuerdo sobre finkatuz ya lo tenemos

firmados en esta cámara en la pasada legislatura ahora lo que queda es operativizar los acuerdos yo no quiero una colección de acuerdos firmados que no sean instrumentos activos para que lo que ahí se refleja

para firmar papeles no hemos venido aquí hemos venido a firmar acuerdos que tengan efectos prácticos no mágicos porque se puede firmar cosas que quizás luego no se puedan conseguir pero sí por lo menos que a partir de ese acuerdo se vea una orientación clara del gobierno hacia el cumplimiento de esos acuerdos porque si no se ve ni siquiera esa orientación entonces bueno puede decir la señora

pero no estamos hablando de lo mismo si luego no hay una voluntad concreta de cumplir el acuerdo y ya está cuando ustedes demuestren esa voluntad pues habrá nuevos acuerdos

lo de las inversiones extranjeras vetadas lo que ha hecho la unión europea bueno se protege

que contra el dumping fiscal por ejemplo y contra empresas que no pagan impuestos de sociedades también hubiera un veto o contra empresas que tienen condiciones laborales esclavistas

desde lo público desde la planificación y ya sabe usted

si gana brasil todo el mundo juega al tiki taka si gana

está ganando china la competición económica mundial y está ganando con planificación

y tímidamente algunos están empezando a dar cuenta cuando llegan los fondos europeos dice hombre igual tenemos que hacer lo mismo porque nos están merendando por las patas entonces sacan los fondos next pero claro tímidamente porque eso supone un cambio de chip y al gobierno vasco le llegan y le dicen oiga ustedes tienen que planificar determinados desarrollos de sectores estratégicos y planificar eso qué es

y no sabemos ni maquetar el documento ni sabemos

por tanto hay un tímido cambio en el signo de los tiempos

las decisiones políticas que están viniendo de estados unidos porque realmente no solo es que china nos esté merendando

está generando en las fracturas sociales de tal dimensión un daño tal al planeta que incluso pues por lo menos los más lúcidos defensores ya

sino que quieran dar estabilidad a un sistema capitalista un poco más sólido están entendiendo

ojalá la lea también y lo ponga en práctica pero ya es el momento de que lo público recobre el protagonismo en planificación y en diseño de políticas y eso es en parte lo que vendíamos diseño público con tres patas con un fondo y un sistema de fondos con una apelación a kutxabank a que cumpla su responsabilidad y también con una banca pública y termino con esto

porque a finkatuz hay que inyectarle dinero desde los presupuestos y entonces haciendo un gran esfuerzo tenemos ahí trescientos millónes

unos recursos muchísimo mayores sin detraerlos de los presupuestos y por tanto puede jugar en otra liga sin hacer que

sí gracias presidenta vamos a ver señor soto la posición de los socialistas vascos es contraria a la propuesta de creación de una banca pública al igual que el gobierno de españa a través del presidente pedro sánchez manifestó en septiembre de dos mil veinte que la banca pública era el ico

pues en euskadi contamos con el instituto vasco de finanzas un organismo que una vez que cuente con el marco legal adecuado

podrá sin limitación realizar prestamos tomar participaciones participar en otros instrumentos como fondos etcétera y además con el objetivo

sobre las pymes las micropymes y sobre el tejido productivo vasco en lo que respectaba a los dos reales decretos leyes mire además de su vigencia de dos meses que es corta para poder

a la que usted apelaba no es un ámbito competencial vasco y usted lo sabe es verdad que alemania francia e incluso españa han protegido

durante la pandemia que el gobierno de españa como bien señalaba elkarrekin podemos izquierda unida pues modificó la normativa que regula esas inversiones

entren en sectores estratégicos aprovechando ese declive bursátil que se había producido a causa de la pandemia pero si no fuera por la excepcionalidad del momento que supone esta crisis sanitaria y esta pandemia la normativa se enfrentaría

y no tendría ni siquiera diez centímetros de recorrido yo creo que de eso usted es plenamente consciente respecto al impedimento de entrada de capital especulativo además del paso que se ha dado que yo creo que es importante señor casanova hombre es difícil a veces intentar reconocerlo pero

que bruselas después de un año consiga un reglamento que habrá que negociarlo con los veintisiete que ya sabemos todo lo que eso supone pero que dé ese paso para evitar la entrada de capital extranjero me parece en empresas subvencionadas por los países de origen a mí me parece

y que debemos de tenerlo en cuenta cada uno en la medida de sus intereses pero al menos los socialistas vascos queríamos dejarlo patente en el debate de hoy porque significa un paso adelante y creo que era importante nosotros pensamos que lo más efectivo es generar trabajar por el mantenimiento

en euskadi de forma práctica con planes con políticas económicas con políticas financieras y como le decía antes generando ese ecosistema de competitividad que a usted señor soto no le gusta le produce sarpullido porque lo ve todo negro pero oiga todo no es blanco ni negro

con elementos que sean claves para el desarrollo del tejido productivo vasco será importante para euskadi y para la ciudadanía de euskadi yo creo que no se puede ver el asunto en blanco o en negro y usted me parece que hoy ha hecho un ejercicio pues ciertamente en fin negacionista total respecto a la cuestión del ecosistema

y luego ya entrando a algunas de las consideraciones que se han dicho en la primera parte de las intervenciones decía el señor casanova tenemos que ser conscientes de la dimensión del problema bueno nos lo dice o no los cuenta porque claro pensar que el gobierno vasco

de hasta dónde es importante el arraigo de las empresas vascas además de las empresas estratégicas pues bueno sería pensar que estamos en los mundos de yupi que no nos enteramos de lo que vale un peine pues sí nos enteramos de lo que vale un peine señor casanova

el arraigo es una necesidad para el desarrollo y la consolidación de ese tejido productivo vasco de las empresas de las pymes de las micropymes pero cómo va a ser un tema de sentimentalismo pero dónde se cree usted que estamos trabajando esto es más serio

por parte del gobierno o por parte de los grupos que sustentamos al gobierno otra cuestión yo creo que decía antes el señor

claro ustedes los grupos que sustentan al gobierno han presentado una enmienda pues no se sabe si de contención porque no plantea nada

con la finalidad de intentar consensuar y llegar a un acuerdo con el promotor de una iniciativa

por parte de quien presentaba la iniciativa por parte del señor soto ni siquiera se nos han dado

así han sido no con lo cual te excluyen de un posible acuerdo supongo que será para que en esta tribuna se fije la posición política

que han llegado a una transacción fijar esa posición y bueno

encontrar eso que ellos le llaman publicidad o marketing por parte

ha estado en disposición de llegar a esos acuerdos y señor casanova ustedes han tenido posibilidad de influir en la negociación presupuestaria en conseguir los fondos que quisieran para poder invertir en eso que nos ha dicho de las cantidades setenta y cinco millónes por aquí tanto por allá

no lo han hecho y esa es su responsabilidad porque cuando pasa ese tren y no lo cogen luego no vale venir en el resto de la legislatura a dar al menos en el año del ejercicio presupuestario a dar la matraca erre que erre con que el gobierno no hace oiga

berriro ere gai hau azaltzen da tercer punto de esta memoria objetivos generales para el año dos mil veintiuno y su cuantificación

formalización de acuerdos y convenios con la administración de la comunidad autónoma de euskadi y con las sociedades de garantía recíprocas de euskadi para instrumentar la financiación de pymes y empresas de mediana capitalización hor daukagu elkargi

que tomará pequeñas participaciones para entrar en el capital de pymes vascas para ayudar a su arraigo

es uno de los treinta y tres socios protectores con el nueve coma ochenta y ocho por ciento de participación y si sumamos las tres diputaciones forales

prestación de apoyo financiero a pymes empresas de mediana capitalización quinto punto toma de participaciones en empresas estratégicas para euskadi

con un capital social fundacional de ciento sesenta millónes y ampliables durante la legislatura a los trescientos millónes de euros y aquí el señor soto nos planteaba que con este fondo no iba a ser suficiente para comprar

el día treinta de junio del dos mil veintiuno este real decreto tiene vencimiento fecha de vencimiento y por qué porque existe la libre circulación de capitales de mercado único europeo

en las que se pueden regular este tema y en el tercer punto son medidas justificadas por razones de orden público o de seguridad pública

el gobierno de españa para firmar este decreto

que se invocó durante la crisis de deuda soberana europea anterior

a fin de evitar una salida excesiva del capital que es lo que ha ocurrido en esta crisis sanitaria chipre eliminó todas las restricciones restantes en dos mil quince y grecia lo hizo en dos mil diecinueve y por otro lado el ecosistema señor soto ha menospreciado el ecosistema que necesitan nuestras empresas para el arraigo y ya se lo ha explicado la señora corcuera pero yo creo que es imprescindible yo he hecho una comparativa

los hinchas del athletic sabemos lo que tenemos muy clara nuestra filosofía y sabemos lo que es jugar con grandes jugadores locales con gigantes mundiales

se puede llegar a tres finales durante el mismo año y se pueden jugar y se puede estar en los puestos delanteros de la tabla solo hay una forma de conseguirlo entrenando y preparando

gobierno trabaja para crear las condiciones que facilitan que estas empresas mantengan ese arraigo y ese compromiso con el empleo con las inversiones y con la actividad

subyaciendo continuamente esta división que la vemos en tantos debates y tantas propuestas entre lo público y lo privado entre las empresas públicas y las empresas privadas el capital público y el capital privado

no vamos a llegar seguramente a ningún acuerdo al respecto hombre yo solamente querría decir dos cosas al respecto una de ellas es que lo público no cae de los árboles

todas las empresas públicas y que todos los fondos públicos y que todo el dinero público sale del bolsillo de los ciudadanos que lo necesitan y que por lo tanto cada vez que hablamos de lo público tenemos que tener cuidado porque estamos tocando el dinero de los demás y en ese sentido

nosotros consideramos como ya creo que todos saben que lo adecuado es un mix un mix entre empresas públicas y empresas privadas en los que cada uno cumpla su papel como pasa

que funcionan bien en el mundo y en ese sentido

o para hacer este tipo de cosas nosotros pensamos que lo que hay que hacer es escuchar a las empresas y si quieren ustedes públicas y privadas porque claro las privadas no son necesariamente las malas hay empresas privadas también con dueños de bildu o de podemos

entonces cuando les preguntamos a esas empresas cuando uno toma el riesgo de montar una empresa de cualquier tipo y se pone en el mercado y se pone a competir

pues las empresas lo que nos dicen es que ese famoso ecosistema que tenemos que crear

ambiente competitivo para que les ayude se reduce a cosas muy sencillas ellos lo que dicen es necesitamos por una parte que nos dejen trabajar necesitamos que no nos cierren necesitamos que siempre y cuando cumplamos la legislación y cumplamos los requisitos adecuados

necesitamos estabilidad y necesitamos seguridad jurídica y todos los

vemos que se caracterizan justamente por este tipo de cosas y luego está el problema de las empresas

para que efectivamente haya más gente que se anime arriesgarse que se anime a competir que se anime a invertir y que en ese sentido pues tomen la opción de por ejemplo en vez de hacer oposiciones que es una opción

puedan tomar la decisión de iniciar empresas que algún día

y para eso ellos dicen cada vez que les escuchamos dicen lo mismo reducir la burocracia reducir los tiempos facilitarnos la creación de las empresas

y así es como creamos un ecosistema realmente competitivo en el que la gente pueda crear riqueza y pueda crear empleo claro la otra opción es efectivamente apostar por el empleo público pero repito eh todo eso
no cae de los árboles todo eso lo pagan los ciudadanos de su bolsillo gracias eskerrik asko

de incertidumbre con la finalización del estado de alarma el próximo nueve de mayo y en este caso tenemos que decir claramente

nuestras vidas a partir del nueve de mayo

porque no obtenemos respuestas de este gobierno no sabemos qué va a hacer este gobierno sabemos que va a aprobar un decreto pero más allá de que va a aprobar un decreto no sabemos cuál va a ser el contenido de ese decreto a día de hoy no sabemos cuál va a ser el contenido exacto y las medidas concretas que va a adoptar este gobierno está claro que además después del informe de la fiscalía

igual que ninguna comunidad autónoma pueden tomar medidas que afecten a la restricción de derechos fundamentales

a derechos contemplados como derechos fundamentales y por lo tanto no pueden tomar medidas en relación al toque de queda o a los cierres perimetrales que afecten a la movilidad

de las personas por lo tanto nada de toque de queda

a partir del nueve de mayo lo que sí nosotros lamentamos

es que a día de hoy otros ciudadanos de otras comunidades autónomas saben qué va a ser de sus vidas a partir del diez de mayo pero aquí no sabemos cuáles van a ser esas medidas exactas

del gobierno vasco en ese sentido pues lamentamos que una vez más este gobierno no esté a la altura de las circunstancias que

certezas que más bien está escondido agazapado esperándolas a verlas venir

behar diren neurriak eta bereziki hartzen diren neurriak eraginkorrak izateko yendo al tema de la moción que nos ocupa que

de plenos de control ya lo dijimos y lo estamos reiterando también en todas las comparecencias ayer mismo

comparece la consejera de salud para darnos explicaciones

este grupo porque esas comparecencias se limitan a dar datos

informe epidemiológico que emite el departamento sobre la evolución

está claro que algo está fallando en euskadi cuando estamos a la cabeza del número de contagios y cuando las medidas que se han adoptado han sido muy restrictivas incluso diríamos que de las más restrictivas

que hemos mantenido y que he mantenido personalmente y muchos de mis compañeros a lo largo de estas semanas y estos días porque entendemos que esa reflexión no se ha hecho o

aunque es cierto que los datos van ligeramente mejorando

la situación sigue siendo crítica especialmente en el sistema sanitario

el martes se produjeron setenta y cinco ingresos y las uci están realmente en una situación

preocupante y eso acarrea y tensiona no solo un esfuerzo de los profesionales sino del propio sistema y genera tensiones como digo en nuestro sistema de salud en osakidetza señalaba que el pasado dos de mayo ocupaban las uci ciento noventa y cinco

como decía si bien la incidencia acumulada ha bajado de los quinientos casos se sitúa en cuatrocientos noventa y cuatro sigue siendo alta y sobre todo si lo comparamos con las cifras que tenemos en el resto de comunidades autónomas en el resto de españa donde se sitúa en doscientos cinco coma noventa casos

habitantes por lo tanto seguimos duplicando en la tasa de incidencia la media nacional y creo que eso sinceramente

reflexión sincera a este gobierno nosotros hemos solicitado y ayer también se lo dijimos a la

que es necesario tener un análisis epidemiológico exhaustivo de dónde se están produciendo los contagios para tomar las medidas más pertinentes y sobre todo más efectivas y en ese sentido a día de hoy tampoco conocemos

produciendo esos contagios qué porcentaje de contagios se están produciendo en el entorno privado en el ámbito doméstico

en el ámbito de la hostelería en el ámbito educativo en el ámbito de por ejemplo del transporte público entre otros este grupo en la pasada interpelación puso de manifiesto las deficiencias o cuestiones susceptibles de mejora que entendíamos en las que había que hacer

este gobierno y son algunas de las que hemos recogido en el texto que hemos planteado hoy como moción en un primer punto hacemos referencia a que

sí nos constan diferencias entre territorios incluso en los territorios entre las propias comarcas y por eso creo que en aras a un principio de equidad estas diferencias pues se tienen que paliar subsanar como no podía ser de otra forma creo que también hay que acelerar el proceso de vacunación en general pero especialmente el proceso de vacunación de las personas de alto riesgo y crónicos de forma inmediata

dificultades para establecer una conexión directa entre la información que tienen los servicios de atención primaria

a la situación de cada paciente que está en

o crónicos y también un análisis de las circunstancias que puedan acreditar que una persona está en esta situación y justifique su pronta vacunación y en este sentido

por otra parte también en muchas ocasiones hemos tenido conocimiento

o se intenta seguir la vacunación por grupos de edad en algunas ocasiones y sobre todo porque ha habido un cierto desorden a la hora de

personas que pertenecen a los grupos ha podido haber como decía cierta descoordinación y no se ha respetado escrupulosamente el criterio de vacunación

de ochenta noventa años aunque son situaciones que también se siguen

a que se respete escrupulosamente el criterio de edad como además nos decía la consejera

es la edad a la hora de establecer las priorizaciones en el proceso de vacunación todos conocemos incluso algunas personas también presentes en esta sala han sufrido las deficiencias en las citaciones y los fallos en la web de osakidetza en ese sentido esperemos que estos fallos no se

y que se subsanen se pongan las medidas pertinentes para que como digo no se vuelvan a producir y también creemos que hay que potenciar los equipos de atención primaria y reforzarlos allá donde haga falta especialmente en la zona rural y una de las cuestiones

también no estamos como deberíamos de estar es en el tema de la red de rastreo creemos que hay que reforzarla este tema es absolutamente fundamental el papel de la red de rastreo para identificar el origen de los contagios y los brotes

y ver exactamente dónde están las zonas de contagio y digo que esta cuestión es sumamente importante porque si conocemos estos puntos concretos

y que den mejores resultados para frenar esta pandemia estas son las cuestiones hauek dira gure mozioan planteatzen

gauzak izan dira en ese sentido hay varias enmiendas a esta moción las presentadas por el grupo eh bildu y elkarrekin podemos

nosotros podríamos matizar algunas de las cuestiones pero sí que entiendo que se han recogido los puntos fundamentales que planteábamos en nuestra

a dicho texto y por otra parte la enmienda de transacción de totalidad perdón presentada por los grupos que apoyan al gobierno

cuestiones que en líneas generales no pueden estar más pero nosotros como siempre que se producen debates en relación a la pandemia

un planteamiento un poco más realista incluso más ambicioso y dé respuesta más exacta a las cuestiones que en este momento

la iniciativa que presentaba la señora garrido desde nuestro punto de vista es cierto que de alguna manera recoge algunas o resume algunas de las cuestiones

la mayor parte de la iniciativa que ha presentado la señora la señora garrido a pesar del título va dirigida

y solo en el último punto a lo que tiene que ver con la detección el control de la propagación del virus respecto a la mala trazabilidad que podemos tener en euskadi

en la crítica a los errores y carencias que nosotros estamos viendo tanto en la campaña de vacunación como en lo que se podría hacer respecto a la lucha contra la transmisión del virus pero lo cierto es que también al igual que la última vez que trajo el partido popular una iniciativa de este tipo

hay otros grupos de la cámara que podemos coincidir pero no hay ninguna intención tampoco

en un documento coincidencias y la verdad es que hoy vamos a debatir sobre

en la comisión le transmitimos a la consejera también las críticas que hacemos los grupos parlamentarios y que las conoce perfectamente y está aquí presente nosotros hemos hecho una enmienda

donde incluimos una serie de cuestiones porque podrían ser muchísimas y de hecho cuando hemos transaccionado con la señora ubera que había hecho una enmienda

una enmienda bastante profusa porque son muchas las cuestiones de las que estamos debatiendo sobre

como lo que tiene que ver con la detección y el control del virus nosotros habíamos hecho una enmienda

en tres o cuatro cuestiones que nos parece importante a nuestro grupo y que simplemente

voy a destacar una es el tema de

hemos dicho posibles agravios comparativos entre territorios a través de las osi básicamente porque esto lo hemos visto en algunos momentos de la campaña de vacunación

sobre todo al principio de la campaña de vacunación cuando ya dijimos que la planificación no era en absoluto buena pues eso dio como resultado también

con cómo se vio en los casos de la vacunación irregular con cómo desde salud pública se suministran las vacunas no había un control muy estricto y esto

ha generado algo de esto luego el tema de los enfermos crónicos aquí es verdad y el otro día en la interpelación

interesante en ese sentido es verdad que en los documentos del ministerio porque los documentos de aquí en esto son un corta y pega

los colectivos de muy alto riesgo pero también es verdad que hay enfermos crónicos pluripatológicos que no están recogidos

en ese grupo y que nosotros pensamos que ahí desde nuestras competencias el departamento podría hacer una valoración más exacta en base a su situación clínica para ver si es conveniente o no es conveniente su vacunación que en cualquier caso nosotros lo que planteamos es que sea lo más lo más pronto posible luego una cuestión que nosotros incluimos y que vamos también a traer a este parlamento

a la consejera que es sobre la vacunación de colectivos de exclusión social personas sin hogar personas de calle colectivos migrantes que es donde es verdad que el gobierno ha dicho

en base al principio de edad al que se ha hecho referencia anteriormente pero que nosotros pensamos que eso necesita una estrategia concreta un poco más

circunstancia por su propia situación además de cierta mayor exposición

a la hora del tratamiento de la vacunación en cuanto a contacto etcétera y ahí

con las diputaciones con las entidades que trabajan habitualmente con ellos nosotros echamos en falta que se concrete esto en un papel cómo se va a hacer nos parece

importante y por eso lo incluimos lo vamos a traer también aquí y luego nosotros hablábamos también

entramos a analizar cómo va la campaña de vacunación y hacemos las críticas a cómo se está haciendo la campaña de vacunación pues vemos una cierta falta de transparencia es verdad que nosotros tenemos a la consejera para preguntar todos los miércoles

no se traga el vídeo de las comparecencias de los miércoles y bueno hemos visto que en muchos de estos aspectos no hay una evaluación no hay una evaluación continua la página web en el apartado donde se titula proceso de vacunación la última actualización

esta misma mañana y por lo tanto aquí pensamos que también hay una falta de transparencia que se debería corregir bien sobre la enmienda que presenta el gobierno bueno nosotros tampoco tenemos nada especialmente en contra de esa enmienda

si bien lo que me parece interesante es que muchas de las cosas tal vez no todas

no son contradictorias con lo que se está diciendo en la enmienda y por lo tanto creo que estamos planteando medidas de mejora o de corrección

que entran perfectamente en ese marco que plantean los grupos que apoyan al gobierno y yo

que creo que no entran en contradicción con ese marco que plantean ustedes

marcado por el ministerio y que perfectamente creemos por lo tanto que podrían ser asumidas por el gobierno lo que tiene que ver ampliar el equipo de y equipos de investigación reforzar la dirección de salud pública con el objetivo

que hemos visto que la carga de trabajo sobre todo en algunos momentos

desde luego la estrategia de vacunación para la población excluida del sistema y o en riesgo de exclusión social a la que me he referido no se escapa de ese marco

refuerzo de los equipos de vacunación para que el personal no esté reivindicando cada poco tiempo que están en una situación de cansancio permanente desde luego no se escapa de ese marco evitaría tener que escuchar como hemos escuchado esta semana

muy saturados la mejora de la gestión de citas evitar aglomeraciones mejorar como se hace la vacunación en esos lugares de vacunación masiva revisar los colectivos profesionales para evaluar medidas de refuerzo de la seguridad ante el contagio

en su enmienda y que pensamos que el gobierno podría asumir perfectamente y que están recogidas en esta enmienda de transacción besterik ez

gracias señora presidenta yo señora garrido le tengo que confesar que cuando

del librillo que nos reparten con la iniciativa porque en los cinco primeros minutos yo he dicho me he equivocado de iniciativa

que veníamos a discutir y yo no es la primera vez que lo digo y hoy lo voy a volver a repetir porque me da la sensación de que cada vez que nos trae una iniciativa sobre vacunación se constata que en todas las comisiones en todos los plenos anteriores hemos tenido un diálogo de sordos en el que no importa da igual los datos que se aporten sobre vacunación sobre rastreo le decíamos ya hace tres semanas le decía la consejera que más del cincuenta por ciento

la propia enfermedad nos da igual los datos

y se viene aquí a soltar lo suyo y a mí es que eso me parece absolutamente contraproducente

del que algunos además tienen el dudoso honor de no querer salir

absolutamente nada nada edificante y además me llama la atención me sigue llamando la atención que no han cambiado de argumentario a pesar de que el escenario de vacunación en euskadi haya cambiado completamente nos dice lo mismo

lo mismo que hace tres meses que hace dos meses lo mismo

salía a defender la necesidad de una estrategia de vacunación adaptativa y me calló la del pulpo por usted sinceramente que esa no era la vía y yo creo que es lo más lógico lo he explicado muchísimas veces hay una estrategia absolutamente clara

acordada que se va actualizando en base a las evidencias científicas que tenemos los nuevos datos con los que contamos y el número de vacunas que vamos recibiendo

y que con ella íbamos a conseguir adaptar la vacunación en euskadi para conseguir los mejores resultados

en lo que usted nos dijo se puede ir al diario de sesiones se puede quien quiera

los datos de vacunación avalan que teníamos razón avalan que teníamos razón y por eso nuestra postura hoy

la que se recogen en el primer punto que es ejecutar la estrategia de vacunación adaptándonos por supuesto

y a las recomendaciones de las autoridades sanitarias dentro del consejo de la comisión de salud pública del consejo interterritorial

porque lo hemos dicho en numerosas ocasiones los socialistas apostamos por acelerar y acelerar y acelerar todo lo que podamos el proceso de vacunación como hemos venido haciendo desde este gobierno en base a las vacunas que hemos ido recibiendo al número de dosis de vacunas y eso ha hecho que hoy consigamos

al que teníamos hace escasamente por ejemplo un mes yo volviendo a la estrategia

interterritorial y referido a la iniciativa que usted ha planteado

de hacerlo y esa va a seguir siendo mi voluntad en este pleno y en la comisión del parlamento vasco que el documento de la estrategia de vacunación ese que algunos grupos niega que exista

los que en estos momentos necesito para esta iniciativa

científica se muestra que la edad es el principal factor de

seguida por ciertas condiciones por lo tanto la edad

responde la priorización por edades que se está haciendo en la vacunación pero no aquí en todas partes y por lo que se refiere a esas otras circunstancias

con la edad y que pueden generar un factor de alto riesgo yo le animo a que vaya a la página doce y trece de esa estrategia de vacunación que también han aprobado las comunidades autónomas

se habla de la priorización de las personas con muy alto riesgo y en él se integran ocho condiciones de alto riesgo ya las conocen se lo dijo además se las leyó una a una la consejera cuando le dio respuesta a la interpelación no se las voy a releer y están en la página doce de ese documento por qué ocho usted se podrá preguntar por qué no más yo le puedo responder lo que dice esa misma estrategia y es que la valoración

en coordinación con las coordinadoras del plan nacional del sida y leo textualmente se ha considerado limitar la priorización de vacunación

que son esas ocho esas ocho y en esa misma estrategia ya se le comentó

y se recomienda que esto es importante también que se vacunen con

y señora garrido eso es lo que se está haciendo en euskadi y eso es lo que se está haciendo en otras comunidades autónomas por tanto vacunación

es el mayor factor de riesgo y paralelamente

vacunar a estas personas que están en esos condicionantes que las autoridades científicas y sanitarias no usted no yo establecen que son los condicionantes de alto riesgo pero en la comisión del catorce de abril también hablamos de los pacientes pluripatológicos

y tal y como se nos informó hay un dato que dijo la consejera que no podemos desconocer el mayor caso de pluripatológicos los mayores casos de

de edades más altas y también entre las de sesenta y sesenta y nueve años

y es que la edad también es un factor determinante para las pluripatologías y para las enfermedades crónicas y por eso se sigue también el criterio de edad y por eso los expertos de la comisión de salud pública coinciden unánimemente en que hay que seguir con ese criterio y yo creo que hay que decirlo claro vacunar vacunar y vacunar y eso es lo que estamos haciendo poniendo todos los medios a nuestro alcance

y articulando mecanismos para llegar a todas las personas y a todas las comarcas para conseguir lo antes posible la inmunidad de grupo

resulta que los plazos se van cumpliendo yo recuerdo lo que el grupo popular ciudadanos ha venido diciendo respecto a los hitos de vacunación que aquí hemos planteado o respecto a los hitos de vacunación que planteó el presidente pedro sánchez el día seis

solo hay que verlo pero es que miren el primer hito lo cumplimos hace dos semanas más vacunados con las pautas completas que personas infectadas personas contagiadas y el segundo hito esta semana cinco millónes de personas inmunizadas con la pauta completa en españa hoy hay un veinticinco por ciento de la población que ya tiene al menos una dosis y en euskadi

colectivo del que deberíamos estar todos orgullosos y orgullosas

que se nos proporcionaron treinta y uno coma cinco por ciento de la población en euskadi con una dosis catorce coma cuatro con la pauta completa

y eso es una buena noticia es que es una buena noticia para todos y yo no sé por qué se sigue empeñado en trasladar otra postura

vacunación para conseguir el siguiente hito y si el ritmo de recepción de vacunas sigue siendo el que tiene que ser a mí no me cabe ninguna duda de que también lo vamos a conseguir

nos toca seguir apelando al cumplimiento de las medidas y recomendaciones por qué porque esa es la vía y ya sabemos que ustedes siguen empeñados en trasladar la idea de caos la idea de cuanto peor mejor al final

en el que nos vamos a mover desde el nueve de mayo ya lo hemos visto en esos cinco primeros minutos que usted nos ha dedicado de esta moción nosotros no vamos a perder ni un minuto en la confrontación nosotros estamos en la búsqueda de soluciones y esas soluciones van a venir de la mano de la vacunación

y de la implementación de los mecanismos de cogobernanza y la coordinación para garantizar la necesaria seguridad jurídica en la adopción de las medidas a adoptar a partir de este

en nuestro segundo punto porque señora garrido claro que hay que buscar seguridad jurídica y claro que todas estas cosas tienen que pasar por los tribunales le planteo una pregunta puede ser de otra manera en un estado de derecho
usted cree que puede ser de otra manera gracias eskerrik asko rico jauna

al poco que no se ponían suficientes medidas para evitar el contagio o que se ponían demasiadas dependía de cada cual poco después el rastreo no era suficiente

o que se hagan seguimientos de variantes con más intensidad y ahora vacunas lo único común de todo esto es que según usted señora garrido todo se hace mal si no peor con las vacunas que si se ponen despacio que no se avisa bien a la gente que hay que poner esta que hay que poner la otra que solo poner una dosis para poner a más gente que cada uno se ponga la que más le guste que se pongan todas a todos sin mirar su edad que si antes los de epoc que los de asma

yo qué sé podía ser de buena intención si no fuera porque vienen

cuyo comportamiento con el covid ha sido desde el comienzo de esta legislatura criticar permanentemente elevar artificiosamente la voz para decir incluso

antes de hacer nada a veces que se hace mal a no escuchar las explicaciones y volver a preguntar una y otra vez aunque se le conteste

porque la oposición está para señalar lo que piensa que hace mal el gobierno si no fuera porque insisto según usted

y eso ya le convierte en sospechosa de criticar solo para la obtención de un supuesto rédito político y no le ayuda a construir que es algo que por si usted

también le corresponde a la oposición de vez en cuando y ante esa estrategia permanente de intento de obstrucción nosotros como grupo que apoya al gobierno pero

por la comprensión de la dificultad de gobernar y de tomar decisiones durante este tiempo centrados ya en las vacunas ya lo he dicho

una semana se podían sacar cinco dosis de cada vial y a la semana siguiente seis así hasta que la ema para la vacuna astrazeneca la para

nos ha oído a nosotros critica todo eso no porque nosotros somos conscientes de que el gran éxito es de que en un solo año

eso es un éxito inimaginable de la ciencia y del ser humano

a partir de ahí van a existir lógicos problemas de carácter técnico pues se han puesto en marcha masivamente sin esperar

sin esperar ensayos masivos que se están haciendo sobre la marcha y así seguiremos hasta que en unos meses el aprendizaje sea lo suficientemente elevado

porque es menor el riesgo de inyectar la vacuna que el de no ponerlas hasta tener la definitiva cerveza certeza

de su absoluta seguridad además siempre nos ha tranquilizado que se actuaba supervisados por organismos de expertos en permanente vigilancia

yo mismo podría ser un gran experto en vacunas por qué no si en vez de haberme dedicado mis principios profesionales a la oceanografía hubiera dedicado a la virología ahora probablemente podría ser un gran experto pero yo

no me atrevería a decir ni siquiera sabiendo muchísimo

o a quién antes y a quién después cuando una materia como esta la colocamos lógicamente en manos expertas que analizan cada hora lo que está ocurriendo lo lógico

y entre las decisiones tomadas por esa comisión de salud pública y su ponencia de vacunas está la del orden de vacunación y ese orden establecido por esa comisión es el que justo

no se producen agravios comparativos entre territorios ni comarcas salvo las lógicas alteraciones puntuales de la distribución o de otras características logísticas respecto a la edad y a las diferentes patologías el gobierno está respetando escrupulosamente el criterio establecido por los expertos en la materia de ponencia de vacunas

de prioridad en el que se incluyen a los de setenta o menos con condiciones de muy alto riesgo y todo eso

no hay ninguna razón social ni política ni de rentabilidad ni de nada es técnica derivada del cálculo de riesgo de enfermar o tener que ser

una idea de cómo vacunar y a quién antes o después pero hay un grupo de expertos que lo determina sigamos su criterio y dejemos de abonar la duda el debate sin conocimiento

donde en principio tendríamos que llamar a la tranquilidad más desconcierto el proceso de vacunación elemento nuclear de esta moción se debe resolver desde las recomendaciones iniciales de la ema

los posibles usos de cada vacuna y la comisión de salud pública organismo que adapta esas recomendaciones y que establece la prevalencia de quiénes deben ser vacunados o tipos de vacunas otra cosa es que a veces debido a las urgencias en la toma de decisiones a los cambios de las especificidades técnicas o también que se reconocen a errores derivados de la complejidad del proceso se produzcan disfunciones puntuales

todos ellos son conflictos derivados de la urgencia y de la que como le he dicho

que se saquen de contexto se les incluya unos altavoces a pesar de lo cual el proceso de vacunación se está haciendo profesionalmente y con eficacia otra cosa

no le guste mucho pues tengo una mala noticia que darles

sino mejor y paso por un momento al rastreo porque ahí ha colocado en su moción varias cosas diferentes que

le concluyo que partiendo del principio de que es más importante retirar de la calle y de la relación social a un positivo que llevar su dato a un registro el rastreo que en euskadi hacen más de setecientos personas se hace muy bien se registra en la base web data se anotan todos los casos y todos los contactos para intentar determinar si ha sido contacto social laboral en la educación

incluso desde el uno de marzo también preguntan a cada positivo

estoy convencido lo sé que se hace muy bien con profesionalidad con retrorastreo de contactos hasta de catorce días que ya es y del

localizado que se ha retirado de la relación social en euskadi se da el dato diariamente y en general más del cincuenta por ciento de positivos vienen de contactos

otra cosa bien distinta es conocer el ámbito exacto del contagio que en algunos casos los menos se puede lograr

ha comido con unos amigos ha tenido dos reuniones de trabajo y ha terminado cenando con su cuñado quién sabe con certeza dónde se ha producido ese contagio lo importante

con nadie y ya por último y no menos importante fundamental

hemos incluido en nuestra enmienda la solicitud para que los gobiernos vasco y español intensifiquen el diálogo y la coordinación para concertar un modelo de actuación a partir del nueve de mayo cuando en principio y parece que en final finaliza el estado de alarma

para detectar positivos la vacuna es imprescindible para alejar la pandemia pero entre tanto

que continúen los contagios y el principal motivo de esos contagios es el contacto social el mejor modo de evitar ese contacto social contagiador es la responsabilidad de cada cual

estamos convencidos de que resulta necesario acordar entre los gobiernos vasco y español la posibilidad de dictar normas que contengan para un tiempo

jurídica para evitar su decaimiento por interposición judicial no se busca enfrentamiento ni conflicto sino que estamos convencidos de que pactar siempre desde el intercambio y el acuerdo

para continuar esta lucha contra la pandemia sin por ello olvidar ni el rastreo y sobre todo las vacunas pero todo

apelo de paso a todos los grupos y estoy terminando ya a todos los grupos de este parlamento a que apoyen la necesidad de este acuerdo de este punto de nuestra enmienda

mientras avanzamos con urgencia a la vacunación de todas

las cosas que no funcionan y que este ejecutivo además lo está haciendo francamente mal señor tellería quiero dejar claro que la crítica siempre es buena y no se puede banalizar con ello de hecho hoy con la voz dañada estoy aquí intentando hacer una crítica constructiva y dando nuestro punto de vista de repente teníamos vacunación masiva

se les dice que tendrán que esperar hoy reservamos dosis mañana ya no hace falta y entre tanto anuncios a través de los medios de comunicación

por supuesto la clave está en la disposición de vacunas eso lo tenemos todos claro pero no se nos escapa que con las vacunas en nuestras manos es la administración correspondiente la que decide qué y cómo y en nuestro caso ese qué y cómo ni se discute con agentes

el tiempo viene demostrando la improvisación de este ejecutivo su tendencia a la improvisación y también

del resto transparencia transparencia y transparencia esa es la solución cuál es el problema para que la información sea accesible a toda la ciudadanía cuáles son las intenciones de este gobierno al insistir en la opacidad y en la ocultación de un protocolo que en ocasiones parece ni existir

hay que vacunar cuanto antes al personal y a los pacientes de mayor riesgo se han de respetar los criterios de vacunación siempre y cuando esos criterios existan y sean del conocimiento de toda la ciudadanía y claro que hay que echar el resto para que las personas

no tengan que pasar larguísimas horas ante su ordenador para conseguir una cita cosa que yo personalmente he comprobado con familiares y que la técnica además es casi

volverán a dar una coartada a un gobierno que no funciona que ha contribuido al triste logro de situar al país vasco a la cabeza de españa en positivos

a pesar de sus muy restrictivas medidas y seguro que además debido a su mala gestión

lo mismo que nos ha llevado a esta penosa situación después lo que vamos a hacer hoy lo tenemos muy claro vamos a apoyar la proposición la moción de pp

lo razonable sería que nada de esto además se estuviera debatiendo hoy después de casi año y medio de tener esta crisis sanitaria en nuestra sociedad

no vamos a ser cómplices no vamos a ser cómplices de los problemas de salud física y mental y de la ruina generalizada que estamos teniendo ahora mismo con esta actual situación gracias

no quiere escuchar bueno señor erkoreka y señora sagardui espero que le trasladen el contenido de parte

y el señor tellería yo creo que hay cuestiones otra cosa es que ustedes no quieran analizar ninguna propuesta de la oposición

cortesía parlamentaria porque están instalados yo creo que en su discurso en su discurso de la autocomplacencia

están instalados y a veces pues también sin duda da evidentes signos este gobierno de estas muestras de autocomplacencia creo que es mala consejera y sobre todo para los tiempos que corren y para los datos que tenemos

sanitarios del grupo que represento quiero respuestas y creo que no solo quiero respuestas sino que me merezco respuestas por parte de mi gobierno porque este también es mi gobierno el gobierno del partido nacionalista vasco y el partido socialista vasco

y el lehendakari también es mi lehendakari y por lo tanto creo que tengo derecho a exigir y a tener

y hoy a día de hoy le vuelvo a repetir yo no sé cómo va a ser mi vida a partir del diez de mayo lo que sí sabemos es lo que ya sabíamos desde el principio

hay determinadas medidas que no puede adoptar porque afectan a ámbitos en los que no puede entrar que son todos los ámbitos que tienen que ver con la restricción de los derechos fundamentales bueno eso lo hemos sabido por parte del gobierno hoy

y a los cierres perimetrales pero es que en otras comunidades autónomas sus líderes y me da igual líderes de distinto signo político esas cuestiones las han aclarado hace tiempo cuestiones como digo que ya estaba meridianamente claro

respeto al estado de derecho claro aquí podemos decir que vamos fenomenal pero todas estas últimas semanas de ciento ochenta ciento noventa personas en las uci que algunas mueren eh algunas fallecen

es decir que la situación yo creo que no se puede obviar en cuanto a los datos

duplica a la media estatal eso no merece un mínimo análisis por parte de este gobierno digo un mínimo análisis por parte de este gobierno sigan ustedes instalados en la autocomplacencia

los últimos en los puestos de vacunación me hablan de las dosis qué pasa que somos más tontos este gobierno es más tonto que no consigue las dosis que consiguen otras comunidades autónomas

será un criterio de escasez de dosis para todas las comunidades autónomas

la comunidad autónoma del país vasco en relación a las dosis que se reparten

miremos al colectivo de las personas mayores de ochenta años la semana pasada

que ustedes los obvian sigan instalados en su autocomplacencia claro que la estrategia de vacunación se están estableciendo unas recomendaciones por la comisión nacional de salud pero que aquí estamos hablando

y reclamar competencias es que la competencia de planificar un proceso de vacunación

claro pero cuándo se ha empezado a vacunar a las personas en situaciones de riesgo

señor tellería sí de sesenta a setenta y cinco años se podía haber empezado a vacunar a este colectivo mucho antes se ha decidido por este gobierno quienes podían entrar dentro del colectivo de personas esenciales mire nosotros estamos orgullosos de osakidetza señor rico pero lo que no estamos desde luego es orgullosos de la gestión

de la sanidad pública vasca ni del departamento de salud y a los hechos

y la realidad pues su realidad no debe de coincidir con la realidad de la calle

qué va a pasar vamos a seguir cerrados a las ocho de la tarde vamos a poder abrir hasta las diez

hay incertidumbre la gente no sabe en la calle y sobre todo yo creo que no podemos frivolizar

que abrir la persiana que tiene un negocio que ya bastante han pasado estos meses

que han sido además que no han tenido las ayudas suficientes por parte de este gobierno

cambiantes con decisiones en el último momento y para finalizar

con atención algunas de nuestras iniciativas que algo ya plantearemos bien y mire señor tellería es que están realizadas

ustedes sistemáticamente esos a los que ustedes no han tenido en cuenta desde el principio dónde está el consejo asesor de enfermedades infecciosas que fue creado ad hoc para situaciones de estas características como una situación de pandemia
por el señor darpón dónde está el comité de vigilancia epidemiológica amaitu jada y las unidades de los territorios históricos por lo tanto

y un poquito también más a los expertos que desde luego creo que tienen razón

gracias señora presidenta decía la señora garrido que estamos instalados en la autocomplacencia y que tenía la duda de si nos leíamos

que no solamente es que me lea las iniciativas sino que me leo y repaso las intervenciones de aquellas comisiones en las que he estado

ustedes desde el partido popular tienen una capacidad asombrosa de decir una cosa

poner dos ejemplos muy claros yo me acuerdo en una comisión

de salud en la que usted le planteaba a la consejera le recuerdo le recuerdo que el gobierno de españa tiene la competencia de coordinación sanitaria

lo dije yo también efectivamente lleva razón claro lo que no puedo entender

que se salte la estrategia de vacunación que hemos pactado en el consejo interterritorial sí sí es que le está pidiendo eso que se salte la estrategia de vacunación acordada entre el gobierno de españa y comunidades autónomas yo ya entiendo que eso de la cogobernanza ustedes lo llevan muy mal lo han llevado muy mal siempre siempre siempre

intentando plantear aquí otros colectivos de alto riesgo diferentes a los que se establecen la estrategia de vacunación usted ya no solamente está yendo en contra de esa estrategia de vacunación acordada es que está yendo contra el criterio científico es que esa decisión la han adoptado precisamente los organismos que aúnan

sanitarias y a los especialistas que pueden dar una valoración mucho más certera que la que usted y yo podamos dar aquí es que es tan simple como eso

en sacar los mismos argumentos que hace tres meses hace dos meses solo hay que ir al diario de sesiones

la hemeroteca de los medios de comunicación y con un

en la vacunación ustedes siguen con lo mismo oiga que estamos por encima sí pero por encima de la media global en estos momentos es que la situación de la vacunación en euskadi se ha ido acelerando conforme las dosis que hemos ido recibiendo y eso ha conseguido que cumplamos los hitos marcados por el gobierno vasco y los marcados por el presidente del gobierno de españa usted ha criticado los dos o sea que tampoco

importa demasiado y claro otro ejemplo de contradicción es el tema de la situación posterior al nueve

por una parte lanzan a presidentes autonómicos del partido popular

para empezar que ustedes no votaron pero acto seguido paralelamente

que si se trae una prórroga del estado de alarma nosotros no la vamos a apoyar

es que yo creo que se demuestra una vez más que a lo que están es a meterle presión a la olla

y yo sinceramente creo que no estamos a esas a mí no me cabe ninguna duda

y todos los que estamos aquí sentados qué somos además de representantes políticos ciudadanos pero aquí venimos como portavoces de partidos tampoco nos arroguemos aquí que somos representantes de toda la ciudadanía en conjunto somos los representantes de toda la ciudadanía vasca claro que sí

ni menos claro yo comparto que se necesita seguridad jurídica por supuesto que se necesita seguridad jurídica pero le he hecho una pregunta que por cierto no ha respondido cabe

en un estado de derecho en la que se planteen que no intervengan los tribunales usted sabe que no usted sabe que no porque intentan trasladar un mensaje de que existe es el gobierno vasco voy a utilizar una expresión que usted ha dicho qué son más tontos

intenta plantear la situación de que aquí está todo claro jurídicamente y no es verdad y usted lo sabe y usted lo sabe porque cuando dice que sin estado de alarma no se pueden hacer determinadas cosas lo cierto es que sin estado de alarma

lo cierto es que sin estado de alarma ha habido aislamientos e internamientos cuarentenas sometimientos a pruebas diagnósticas limitaciones o restricciones de circulación

informe del consejo de estado para precisamente la impugnación ante el tribunal constitucional de la ley antipandemia de galicia

y mientras eso a nosotros donde nos va a encontrar siempre y en todos los gobiernos es en la búsqueda de seguridades jurídicas y de dar certezas y no más dudas a la ciudadanía

egun on berriro guztioi señora garrido cómo que no leemos nada

sí le voy a decir una cosa y se la voy a demostrar usted no escucha o hace como que no escucha ya estoy canso ya estoy canso porque entre otras cosas nos ha dicho

gobierno no se asesora por técnicos digamos buenos primero

como si el debate que hacemos entre nosotros abogados biólogos maestro y filósofo sean expertos si no tenemos ni idea de la historia

y además ha dicho es que no están los miembros de no sé qué ayer preguntó lo mismo en la comisión

y aquí lo ha vuelto a traer hay tres miembros del consejo asesor de enfermedades infecciosas entre ellos su presidente y un miembro de la comisión del consejo asesor de vacunación en euskadi están

o nos miente o tiene un problema de otitis y luego

por mucho que le diga el decreto por mucho que incluso los jueces y los fiscales decidan lo que sea en el fondo su vida no va a ser no sabe ahora qué va a ser de su vida el diez de mayo ni yo sé

pero esa es la cuestión solo un segundo señora ubera

informa sobre las vacunas no decide sobre las vacunas decide cada estado que le toca y a veces atienden

hable con los franceses y los alemanes ya verá cómo se saltan esas cuestiones es decir que hay que diferenciar los ámbitos en los que trabaja cada organismo en este tema y señor hernández

entre lo que ponen y la nuestra en el fondo aunque hay una cosa que no nos gusta nada tal como lo trasladan ustedes parece como que no se hace

se está haciendo ustedes pueden matizar lo que quieran pero se hace

porque no todos los de sesenta y cinco en todo euskadi a la vez se les vacuna el mismo día

eso no es un problema es decir se está haciendo bien en todos los riesgos catalogados y en los crónicos catalogados es lo que se está haciendo que son trasplante hemodiálisis cáncer vih o síndrome de down de más de cuarenta años de edad esos son los que ha decidido la comisión de salud pública que son los que hay que hacer ahora y esos son los que se están haciendo ahora

no por el riesgo de enfermar lo tienen mayor o menor si fuera solo por enfermedades digamos crónicas

no por cronicidad y no protesto y no protesto otra cosa es que ustedes le pongan altavoces yo mire señora garrido en el fondo usted está imitando ayer nos hizo unos minutos de publicidad gratis sobre lo que ha pasado en madrid y usted lo que está haciendo es imitar a su partido en madrid se ha ido hacia atrás mucho más atrás de la revolución francesa

ya ha pasado a la revolución francesa las disparidades se convierten en encontrar problemas para todos

parece sutil pero es una gran diferencia para usted siempre hay un contrario que es el gobierno vasco y los grupos parlamentarios pero

ustedes los del pp son la conclusión de lo que les gusta en madrid que es lo malo conocido les gusta lo malo conocido

que el otro día dijo en esta vida o das pena

yo no sé si usted tiene envidia de un grupo tan grande como ese es probable que sí lo que sí está claro es que su partido ya con cuatro parlamentarios da pena y por cierto

porque le está contradiciendo a su presidente iturgaiz que le pidió al lehendakari que se vacunara cuanto antes ya

y por último creo que es imprescindible y quiero hacerlo en nombre de todo el grupo nacionalistas vascos animar

para que sigan haciendo lo que están haciendo y que por mucho que les digan sepan que este grupo

steam arloak erreferente falta izugarria

inspira steam proiektua

vivimos en plena transición en plena transición entre la economía y la sociedad de la información la que denominábamos tres punto cero

cuatro punto cero que se caracteriza por la desaparición de fronteras entre lo físico

las tecnologías han venido a cambiar nuestra vida nuestra forma de vivir de trabajar y de relacionarnos los usos y la adquisición de las competencias digitales tienen una influencia enorme sobre las presencias y ausencias de mujeres en la sociedad digital

los últimos estudios e informes de la comisión europea y de la oit el desajuste

y las necesidades del mercado constituyen uno de los principales problemas de nuestra economía algunos de los desajustes están basados en que el sistema educativo está excesivamente especializado y además dedicado a memorizar y a competir entre diferentes campos del saber

por la capacidad de generar ideas nuevas de resolver problemas

y la complementariedad entre distintos campos del saber los organismos internacionales por esto recomiendan que a la hora de diseñar políticas de inclusión digital se realicen estudios

la calidad y la dimensión simbólica del uso de las tecnologías por parte de las mujeres eta hori gaurko ekimena dakarrena

diferentes estudios coinciden en señalar que para superarlas es todavía un reto que requiere políticas y acciones que aseguren la igualdad de género en el acceso a los recursos disponibles en internet este aspecto es fundamental

de participar en el diseño y desarrollo de productos y servicios tecnológicos además de la importancia de que en el diseño de políticas públicas se tenga en cuenta la heterogeneidad de situaciones y perfiles de las mujeres en cuanto a la formación las últimas

de hecho si repasamos los datos sobre participación de mujeres en estudios universitarios en este sector observamos importantes brechas de género en el tipo de estudio que eligen las mujeres y esto lo conocemos prácticamente todas

mientras que los chicos son más propensos a ciencias puras ingenierías tradicionales en cuanto a digitalización y empleo unos datos

ocupan puestos técnicos y especializados solo un diez por ciento bueno casi un once de las empresas contemplan algún tipo de programa o política

solo el diecisiete por ciento lo cumplen las mujeres gizon eta emakume adituek behin eta berriro azpimarratzen dute

de dos mil dieciocho de participación en la creación de tecnologías de la información y la comunicación este es otro ámbito que habría que abordar en la ponencia porque hay una escasa presencia de mujeres en el diseño y producción de tecnologías muchas de las tecnologías desarrolladas hoy en día no contemplan la opinión los intereses y prioridades de las mujeres y ni a que haya entre otros aspectos

especialmente en todo lo relacionado con la inteligencia artificial teknologia digitalak diseinatzen eta ekoizten direnean behar beharrezkoa da generoaren oinarri eta irizpide etikoak betetzen direla ziurtatzea y en este punto todas podemos visualizar

de género presentes en los sistemas de reconocimiento de imagen y voz donde la mayoría están reproduciendo voces femeninas relacionadas con la ayuda los cuidados o los sistemas de algoritmos que en su mayoría también están creados

y aterrizando en la iniciativa que nos trae hoy aquí pues decir

y que se conozca la postura de los diferentes grupos sobre este tema desde elkarrekin podemos izquierda unida hemos llegado a un acuerdo

lore martinezi gure ekarpena jasotzeagatik la enmienda de los grupos de partido nacionalistas vascos y socialistas vascos

una vez más vaga y diluida y no aterrizada con el objeto concreto de la iniciativa el centro de la iniciativa es crear la ponencia

para impulsar lo que aquí se proponía ni siquiera encontramos alineación con el plan de ciencia tecnología e innovación de euskadi

la promoción del talento y de la mujer investigadora bukatzeko gogora dezagun nazio batuen erakundearen arabera

porque hasta ahora son sectores muy masculinizados y se está perdiendo se están perdiendo las capacidades de las mujeres también tenemos que superar los prejuicios que impiden que las niñas y las jóvenes elijan estudios relacionados con la ciencia y la tecnología

a mujeres referentes líderes en campos tecnológicos hay que cambiar la mentalidad de la sociedad por último que las mujeres

y cargos de responsabilidad en los sectores tecnológicos porque son estas las carreras profesionales más valoradas y mejor remuneradas y si las mujeres se quedan al margen

presidenta en esta iniciativa vamos a hablar de igualdad en concreto respecto a la participación efectiva de las mujeres ctiam en la transformación digital de la comunidad autónoma vasca

en una sociedad cada vez más digitalizada y para que se materialicen esos avances tecnológicos hacen falta y van a hacer falta en los próximos

artes y matemáticas debido fundamentalmente al creciente ritmo del desarrollo tecnológico que vivimos

en los que las habilidades y competencias que requieren los profesionales están evolucionando a gran velocidad incluso en aquellos sectores menos tecnológicos

a nivel europeo una gran importancia a la educación

poniendo en marcha sus propias iniciativas y programas educativos stem con el objetivo de fomentar

a todos los niveles educativos desde las edades más tempranas la etapa universitaria la educación stem es aquella educación que integra la ciencia tecnología la ingeniería y las matemáticas en conexión con las artes y humanidades con el objetivo de despertar el interés del alumnado por

profesiones desarrolla competencias básicas tanto transversales como disciplinares y empodera al alumnado a enfrentarse de manera responsable

de educación busca provocar intencionadamente situaciones que permitan

en contexto práctico de diseño y resolución de problemas tal y como se hace en ingeniería de las empresas la propia unesco establece en su informe science education que la capacitación en ciencia y tecnología

considerado esencial promover la educación en estos campos en todos los niveles educativos y mejorar la educación científica de la sociedad en general asimismo incide en la necesidad de prestar especial a animar a la juventud a desarrollar carreras profesionales en el ámbito de la ciencia y la tecnología y en especial a las mujeres por eso

política y en esto mi grupo parlamentario está completamente de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo

de tener que crear una ponencia para determinar las hojas de ruta para elaborar

integral que garantice la participación efectiva de las mujeres

porque dentro de las prioridades políticas está ya incluida la importancia que tiene este reto

diferentes actuaciones contamos con un plan de coeducación que da una gran importancia a esta cuestión y además euskadi y el gobierno vasco consideró de gran importancia la necesidad de dar impulso a la educación stem

una de las líneas prioritarias para este departamento desde el dos mil dieciocho y desde el dos mil diecinueve euskadi participa junto con

diecisiete países en un proyecto europeo de impulso a las vocaciones y profesiones stem a través de la estrategia

y como también se ha dicho los fondos next generation dan una gran importancia en la transformación digital la implantación de esta estrategia

impulsar la educación y formación científico técnica entre el alumnado vasco de todas las etapas educativas poniendo especial atención

en ellas las denominadas profesiones stem y a esto hay que hacer referencia también a que

que el alumnado ha de trabajar dentro de estas actividades competencias como la capacidad de trabajar en equipo habilidades comunicativas o la creatividad

ante esta circunstancia parece necesaria la intervención en la gestión del conocimiento insistiendo en procurar al alumnado estrategias para que pueda establecer relaciones interdisciplinares así como el uso adecuado de este conocimiento para resolver situaciones cada vez más complejas en este sentido se pretende generar intencionadamente situaciones que permitan aprender de manera

en un contexto práctico de diseño y resolución de problemas y por ello el departamento de educación propuso la herramienta también

como un recurso de ayuda y apoyo a disposición de la comunidad educativa

y la atracción del alumnado hacia este tipo de entornos en tanto en cuanto son fundamentales para el desarrollo personal y social de ellos para ello

contiene una ejemplificación que apoya diseño de planes stem para todos los ciclos y etapas y sirve de guía

en cada centro y así se facilita que el profesorado de cada centro ordene y articule el tratamiento del ámbito steam a partir de

para incidir en la motivación del alumnado para comprender obtener y gestionar la información necesaria para lograr la adecuada resolución

se están tomando medidas y estas políticas están en nuestra agenda política de eso no hay duda por eso consideramos

la creación de esta ponencia que marque desde este parlamento las directrices a seguir dentro de un plan estratégico integral específico en este área porque además y ya está tenido en cuenta no solo dentro de las

de coeducación y por ello por lo que era difícil llegar a un acuerdo dentro de este punto porque evidentemente o

o no estás de acuerdo en crear la ponencia no en el fondo de la cuestión que evidentemente yo creo que todos los grupos políticos

efectivamente la importancia que tiene esta materia y es por ello por lo que planteamos

porque consideramos que teníamos que apoyar nuestra enmienda a la totalidad y dentro de la misma

y formación científico técnica en todas las etapas educativas inspirar aspiraciones profesionales en el ámbito steam desde la educación infantil

para preparar al alumnado adecuadamente ante estos retos futuros y promocionar la divulgación y cultura científico técnica entre la

de las mujeres y su contribución social histórica como uno de los pilares básicos del plan de coeducación nada más y muchas gracias

efectivamente existen profesiones masculinizadas estereotipos de género y la falta en algunos casos de referentes femeninos en los ámbitos de la ciencia

que generan que las mujeres difícilmente barajen la posibilidad de acudir a este tipo de estudios ni orientar desde esa perspectiva su posterior desarrollo profesional la menor presencia de las mujeres en profesiones más direccionadas hacia la ciencia

ya que este caldo de cultivo propicia precisamente que desde edades muy tempranas las niñas descarten con facilidad la existencia de un espacio para ellas en estos ámbitos y es ahí donde creemos que debemos centrarnos

desde la educación infantil con especial atención en las alumnas

zabalik dagoela demostretako como he comentado con independencia de actuar desde la base o desde la raíz de la cuestión

acabo de mencionar el gobierno vasco tiene muy presente la incorporación de la mujer a estos ámbitos científicos y así lo podemos comprobar en el propio programa de gobierno

ez dela aipatuten baina aipatuten da dentro de las actuaciones del gobierno que impulsan la transformación digital bertan aipatuten da be bai

del departamento de desarrollo económico sostenibilidad y medio ambiente menciona y propicia esta participación de las mujeres potenciando las vocaciones

porque el empoderamiento e incrementar el protagonismo de las mujeres en todos los sentidos debe ser transversal y este gobierno lo tiene muy claro a la vista está

bat emakunde tiene un papel muy importante en el empoderamiento y la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad

y el empoderamiento de las mujeres siendo uno de sus ejes prioritarios propicia esta igualdad entre hombres y mujeres también en el ámbito profesional

en aras a una mayor participación de la mujer en el ámbito profesional en general y en empresas dirigidas a la innovación y digitalización en particular

protagoniza se puede palpar en las conclusiones del diagnóstico realizado por el instituto vasco de la competitividad sobre la mujer en la transición digital en euskadi

sitúa a euskadi en la octava posición seis puntos por encima de la media europea y este índice ha ido mejorando a lo largo de los últimos años argi dago eta diagnostiko honek

fondo de la cuestión de la iniciativa presentada por eh bildu

necesidad de impulsar la participación de la mujer en determinados ámbitos y sobre todo teniendo en cuenta la importancia de la digitalización como sector estratégico y que efectivamente hay un déficit de las profesionales

en ámbitos concretos como la ciencia la tecnología la ingeniería y las matemáticas en definitiva en el sector científico técnico y que obviamente de cara al futuro y sobre todo teniendo en cuenta los datos también de la propuesta originaria me remito y a muchos de los datos

intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra sin duda

nicho de empleo de cara al futuro por ser un ámbito

económico hay ámbitos claramente que están muy masculinizados y sin duda nosotros creemos que hay que remover los obstáculos que impiden acceder a dichos puestos no hay más que ver las cifras que también se han dicho aquí que corresponden a especialidades como la mecánica y la electrónica

es importante impulsar lo que tiene que ver la capacitación en estas áreas impulsar también la educación y formación científico técnica en las distintas etapas educativas en ese sentido bueno nosotros como decía no presentamos enmienda porque

puede haber otras vías y sobre todo el gobierno vasco teniendo competencias en esta materia y teniendo un margen de actuación claro y sobre todo teniendo en cuenta también los compromisos adquiridos tanto por el lehendakari como por este gobierno

y que hay cosas que hacer y en ese sentido no tengo mucho más que añadir apoyaremos la enmienda presentada por los grupos que apoyan al gobierno

intervención evidentemente la importancia que tiene llevar a cabo políticas dirigidas al fomento de estas

y se pusieron en marcha ya medidas en la anterior legislatura nosotros

le damos una gran importancia a eso por eso también en el programa de gobierno como bien ha dicho la señora ipiñazar el partido nacionalista vasco y el partido socialista

la necesidad de fomentar precisamente estas políticas dirigidas al fomento en las mujeres

señora garrido agradezco su apoyo a nuestra enmienda a la totalidad porque demuestra que todos los grupos que hemos intervenido en este punto estamos de acuerdo en el fondo en la necesidad de impulsar la capacitación en estas áreas y el fomento de la incorporación de las mujeres en profesiones ctiam

señora gonzález dejemos al gobierno vasco que desarrolle y siga aplicando sus políticas de apoyo en esta materia ustedes lo que quieren con la ponencia es que se enmarquen desde aquí las directrices que se tienen que trasladar

acciones se están realizando políticas dirigidas precisamente a la consecución de este objetivo y por eso nosotros

a un acuerdo aunque en el fondo evidentemente como he señalado todos los grupos que hemos intervenido estamos de acuerdo en la necesidad de adoptar políticas que impulsen precisamente la participación de las mujeres en las profesiones

no es la primera vez que hablamos aquí de alojamientos dotacionales y no es la primera vez

para encontrar o más bien pagar una vivienda digna algo se ha debido de hacer mal y no es la primera vez que me escucháis decir estas cosas algo se ha debido de hacer mal cuando llevamos un retraso

al resto de europa y se han dado pasos y es bueno dar pasos

de las políticas adoptadas para ver si van en el camino y solucionan los problemas de los vascos que en su momento contemplamos para poner en marcha este tipo

a la vista queda y a la vista de todo el mundo nos damos cuenta falla y de que no conseguimos encontrar la solución para paliar los problemas que encuentran las familias de hoy en día para encontrar una vivienda digna para llegar a pagarla antes de ayer leímos todos en prensa que se han detectado bueno se han concedido más de cuatro mil a cuatro mil familias se les ha concedido el derecho a el reconocimiento a una vivienda digna

las personas las familias que no consigan una vivienda de alquiler social pues se les reconoce una pcv

cuál es el problema el problema es que ya lo ha dicho el señor

para una unidad convivencial se calculan los nueve mil euros de ingresos para una unidad convivencial de una persona

y una unidad convivencial de tres son quince mil euros y vamos a hacer la cuenta de la vieja los números

al año y está solo bueno pues puede

o entrar en un ad puede llegar a vivir y a comprarse la comida

y ganar esos nueve mil euros anuales cuando son dos

puede llegar a ser el precio bajito y puede vivir pero cuando ya son tres los miembros de la unidad convivencial

y esto es así y ustedes me dirán menos da una piedra nosotros hemos sentado las bases para intentar ayudar a las familias que pueden llegar a estar en riesgo de exclusión y que pueden llegar a no tener una vivienda digna nosotros les estamos dando ayuda estamos

pero cuál es el problema que hay más familias que no entran en ese rango de acción que van a seguir teniendo dificultades

y no hacemos nada porque no nos hemos replanteado por completo el sistema de ayudas sociales en euskadi nuestro grupo

diciendo que debemos hacer una reestructuración un replanteamiento de las ayudas sociales para dar lo primero que necesitan las personas que es una vivienda digna porque está muy bien

intentar que haya una regeneración de la pirámide poblacional

de más de una habitación porque no podemos pagarlas es que todo esto es un círculo y yo entendiendo que desde un punto de vista muy distinto

y que tenemos voluntad de solucionarlo yo mi enmienda iba en el sentido

y en esa labor lo que tenemos que hacer es crear excepciones como las que se vienen a pedir hoy en esta

leyendo la transacción a la que han llegado los grupos que el pnv pse bildu y podemos nosotros vamos a apoyarla

en estos momentos es lo que tenemos que hacer para no dejar a las familias con la angustia de no saber dónde van a obtener sus bienes

dónde van a poder dormir dónde van a poder hacer su vida en los próximos meses en los próximos años pero lo que ha quedado claro y lo que ha quedado latente que realmente

para darles tiempo a reorganizarse a tener un asentamiento laboral que les permita acceder al mercado libre

entonces la forma de abordar la problemática de la vivienda en euskadi no lo estamos haciendo bien y creo que habría que darle una vuelta completa

en esa reestructuración nos encontrarán y podremos avanzar

a familias y familias que no saben a las que se les manda una carta para decirles que tienen que salir de una hada inmediatamente porque han cumplido un plazo porque la vida no se mide en plazos si no se mide en experiencias y necesidades por lo tanto

de la transacción a la que han llegado al acuerdo pero con una reflexión global

ayudar a nuestras familias a vivir mucho mejor gracias eskerrik asko larrea

tenemos una contradicción latente en euskadi con estas viviendas ya que tenemos la ley de vivienda del año dos mil quince pero hay una normativa anterior

dotacionales en el año dos mil seis y también el decreto de dos mil ocho que no se han actualizado con la nueva

generan contradicciones nuestra opinión desde elkarrekin podemos izquierda unida es que debe prevalecer en todo caso la ley de vivienda por encima del decreto que se establece cinco años de estancia en ese tipo de alojamientos que sabemos

son alojamientos provisionales como ya se ha explicado aquí pero

a otro tipo de consideraciones que son de inferior rango en este caso a través de un decreto es decir

material humana y también jurídica de las personas que reúnen las condiciones para ser beneficiarias del derecho subjetivo a la vivienda si no hay otra vivienda

en ese alojamiento nos parece la verdad una situación absurda conceder una prestación

otra vivienda por mucho que estemos hablando de alojamiento estamos hablando de un hogar para esas familias un hogar

en realidad nos importa satisfacer los derechos de esas personas si fuera como en otros casos pocos pero pasan de prestación a vivienda lógicamente

que ir implantando pasar de la prestación a la vivienda pero no tiene sentido perder un alojamiento un hogar por un decreto que insisto es de inferior rango que la ley de vivienda que reconoce el derecho subjetivo

además instábamos al departamento a garantizar el derecho subjetivo a la vivienda de las personas que así lo tengan

los requisitos para que se les conceda siguiendo para ello el artículo

la ley de vivienda y no aplicando como decía la normativa reglamentaria si vulnera el tenor literal de esa ley además como decía y como se ha explicado los alojamientos dotacionales son

de siete años pero vuelvo a insistir que de cinco años perdón pero debo insistir que no se debería de aplicar si la administración no puede garantizar

en esa vivienda y por poner un ejemplo la ley de arrendamientos urbanos ahora sí establece siete años en el caso de que los alquileres sean de entidades jurídicas entidades jurídicas pero creo que me dicen que no bueno de todas maneras

al acuerdo sí que nos hubiera gustado que no apareciera en ese acuerdo esa frase de en la medida de lo posible sino que se debería de garantizar siempre que no haya una alternativa habitacional

que pierden ese alojamiento y que tienen bien reconocido el derecho o tienen la capacidad

no puede ser que por un motivo socioeconómico alguien que no tenga otra alternativa se quede privada de un alojamiento en euskadi

que este acuerdo sirva para impulsar la acción de gobierno en este tema sabemos y lo ha explicado también el grupo

que al menos no se han producido desalojos forzados en este tipo de viviendas pero sí que ha habido problemas

con avisos con cartas que a la gente le

tensa porque es normal porque están hablando de su vivienda

aunque no tenga la categoría legal de vivienda pero estamos hablando de hogares y lo mismo también con el

creemos que en nuestra enmienda éramos más concretos pero bueno esperamos y así también lo dice

este tipo de alojamientos dotacionales en base a lo que está previsto también en la propia legislación y que

entre todos los mecanismos se busque garantizar los derechos de forma permanente sin tropiezos por el camino porque no podemos

dotacional a una vivienda o a una situación de incertidumbre es lo que tenemos que

socioeconómicas muy vulnerables como todos y todas conocemos por tanto

lógico y normal apoyamos este acuerdo un acuerdo concreto un acuerdo sencillo que busca

en sus puntos impulsar la labor del gobierno y sobre todo garantizar

hogares de esos alojamientos dotacionales y que necesitan necesitan de ese apoyo desde las instituciones públicas para poder seguir desarrollando su vida en condiciones

que tienen su origen en la ley vasca del suelo y urbanismo del dos mil seis

distinto de las tradicionales viviendas sociales en alquiler protegido tanto desde el punto de vista de sus características técnicas y tipología como de la gestión del propio alquiler con los alojamientos dotacionales se quería propiciar la innovación tanto en su diseño como en su uso

en lugar de renta se paga un canon por su ocupación y consumo de servicios no posibilita la residencia permanente y tienen un carácter rotacional con una estancia limitada temporal para una misma unidad convivencial de cinco años la pretensión era y sigue siendo por tanto la de promover un producto distinto

emancipación de los jóvenes situación de emergencia como puede ser el caso de las mujeres víctimas de violencia de género

a residencia permanente de unidades convivenciales no se dispondría

que requiere un techo durante un tiempo limitado pero inmediato su carácter rotacional estaba y está en relación directa con el carácter dotacional de los equipamientos a largo plazo es perfectamente posible que los ayuntamientos

una buena solución estructural para siempre o al menos no tienen legalmente esa garantía de permanencia por tanto los alojamientos dotacionales tienen perfecto encaje

destacado de la política de vivienda destinado a dar soluciones más inmediatas a problemas acuciantes

especiales de demandantes pero de manera temporal dando así un tiempo para resolver cuestiones más de fondo a través de soluciones más estructurales en forma de parque público permanente en alquiler este carácter de solución temporal es sistemáticamente

y saben por tanto que a los cinco años como máximo se devenga la necesaria rotación no hay desconocimiento de la realidad como mínimo seis meses antes del fin del contrato se les informa y si optan por demandar de nuevo vivienda pública a través de etxebide

en el alojamiento posibilitando así su acceso en caso de concurrir las circunstancias requeridas

consistencia a sus opciones reales en las nuevas adjudicaciones de alquiler

en la inscripción es un requisito relevante en la baremación empleada en los procesos de

finalmente y desde la entrada en vigor de la ley de vivienda se asume siempre el compromiso de realojar a aquellas personas que tienen reconocido el derecho subjetivo y viven en alojamientos

dos mil dieciocho dos mil veinte podemos tener una buena radiografía

que hemos liderado los socialistas vascos en el gobierno de coalición tanto en la pasada legislatura como en la presente dos mil veinte el último año de ejecución del plan ha estado marcado por la pandemia y sus efectos sanitarios económicos y sociales

excepcionales encaminadas a paliar estos efectos a las personas en situación de vulnerabilidad económica medidas tales como la exoneración del pago de los alquileres públicos

dos mil veinte ha condicionado por tanto los resultados del año y los globales del plan pero aun así en términos generales el cumplimiento

para que nadie se quede atrás en este periodo se han construido dos mil cincuenta y tres nuevas viviendas de alquiler el setenta y cinco por ciento

en este punto no se ha cumplido porque la iniciativa privada y los entes locales no han cumplido con sus objetivos previstos el programa bizigune ha superado el objetivo previsto de seis mil cuatrocientos viviendas vacías captadas

en el año dos mil dieciséis cuando los socialistas entramos a gestionar

las ayudas a los hogares más vulnerables en forma de prestación complementaria de vivienda y prestación económica de vivienda han superado ampliamente el objetivo que era de veintiocho mil setecientos cincuenta personas receptoras situándose

los hogares con derecho subjetivo a la vivienda reconocido han sido seis mil ciento treinta y siete un ochenta y ocho por ciento de los siete mil previstos el parque de alquiler protegido

lo que supone un treinta y tres coma seis por ciento del parque de vivienda en alquiler en euskadi esta cifra está muy por encima del objetivo establecido que era de veintidós mil viviendas

del veintiséis por ciento la cesión de viviendas a organizaciones del tercer sector y otras administraciones

habitacionales ante el lanzamiento ochenta y uno lo que supone un ciento treinta y cinco por ciento del cumplimiento y frente a la violencia de género

un ciento cincuenta y cinco por ciento de cumplimiento se han situado todas ellas claramente por encima de los objetivos fijados además en dos mil diecinueve

llevamos de legislatura entre el dos mil catorce

viviendas protegidas de alquiler y euskadi es la segunda comunidad autónoma que más inició

que prácticamente nos triplica el número de habitantes en términos relativos cabe destacar que entre dos mil catorce y dos mil veinte

dos coma seis viviendas protegidas por cada mil viviendas principales ratio superior al registrado en el resto de comunidades autónomas la segunda es navarra

que una vez más desde luego pone de manifiesto el liderazgo de los socialistas vascos en la puesta en marcha de políticas efectivas de vivienda

la puesta en marcha de alternativas para que aquellas personas

tengan una alternativa habitacional cuando las circunstancias empeoran desde luego que creo que es importante el acuerdo que hemos alcanzado

acuerdo transaccional y es importante que otros grupos que no lo han firmado también se sumen pero después de escuchar la intervención de la señora larrea me ha quedado una duda a mí me gustaría conocer cuál es la fórmula de la dureza que propicia que ustedes tengan

se permitan darnos lecciones a nosotros sobre el derecho o sobre el acceso sobre requisitos para acceder a una vivienda que tiene reconocido

cómo ustedes se permiten darnos esas lecciones cuando ustedes precisamente fueron un grupo que se opuso al reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda cuando ustedes precisamente se opusieron a que en euskadi tuviéramos una ley de vivienda que precisamente

posibilita que los ciudadanos y ciudadanas de este país tengan ese derecho por favor me gustaría conocer cuál es la fórmula porque desde luego sería

claramente que cuando me refería a los nueve mil doce mil y quince mil euros de ingresos sabía que era el baremo que se tiene en cuenta para

lo que quería decir y quizás no me he expresado bien es que es un baremo bajo nos conformamos con poco pero no pasa nada estamos para mejorar

que la mejora continua lo dije hace un tiempo es una de las claves de mi forma de trabajar

señor andueza yo llevo poco en este parlamento pero me voy dando cuenta de cómo van funcionando las personas a usted le gusta entrar en la descalificación no me conoce de verdad y no tengo la piel dura no pasa nada yo se lo admito cada uno tiene su carácter yo soy más tranquila le puedo decir

se votó en contra no solo por parte del grupo del que yo formo parte

es una ley que sale adelante nosotros la asumimos porque formamos parte de la sociedad vasca tenemos que asumir todas las leyes que salen pero una vez que están

pero le molesta que se evolucione le molesta pues parece ser porque se siente usted dolido a cada vez que hago alguna intervención que no va en el sentido en el que usted espera

estamos para mejorar el partido popular y ya dejando este tema yo el partido popular ciudadanos porque estoy hablando ahora mismo

que se hacen cosas que se han hecho pero no pasa nada por decir que se tienen que mejorar las hadas son alojamientos dotacionales para jóvenes en el que es difícil vivir cuando ya se tienen hijos lo ha dicho la señora berasaluze claro que sí pero también es cierto que a las familias hay que darles una oportunidad a las personas hay que darles una oportunidad para poder incorporarse

este gobierno que tiene la competencia de vivienda tendrá que hacer todo lo posible para construir

necesarias para alojar a estas personas y tendremos que hacer un esfuerzo y en ese camino nos vamos a encontrar

se trata de poder llegar a acuerdos y la política es una constante evolución y se trata de afrontar un problema real de los ciudadanos de euskadi y ahí nos vamos a encontrar

y le voy a decir otra cosa usted se siente muy a gusto cuando habla de los objetivos que han conseguido

que se ven con la dificultad de no poder acceder a otra vivienda porque tienen dificultades económicas o porque su baremo económico no llega

y con los doscientos cincuenta euros que se les da de pcv cuando se reconoce el derecho subjetivo a la vivienda no les llega para encontrar otra cosa su satisfacción no les va a hacer estar más tranquilos

de llegar a un acuerdo desde luego yo también agradezco al resto

de alcanzarlo y eso da también buena muestra de que hay grupos parlamentarios que vamos en la buena dirección en el intento de mejorar nuestros instrumentos y nuestras herramientas para que nadie se quede atrás no creo que tengamos un problema

el deber moral y la necesidad de intentar mejorar al máximo para que efectivamente ni una

ningún tipo de dificultad señora larrea mire a mí no me molesta cuando alguien discrepa con lo que yo opino es más cuando

en mis ideas me empezaría a preocupar que yo pensara igual que ustedes porque entonces eso significaría que ya no voy de acuerdo a mis ideales pero hombre

y que se venga aquí con un discurso demagógico a decir cosas que no son y a mí me parece muy bien que usted quiera venir aquí

en el que todo le puede parecer estupendo pero la realidad es la que es y ustedes votaron lo que votaron aquí

tan objetiva que a ustedes de alguna manera les impide venir aquí a hacer determinados discursos usted no puede decir que nos conformamos con poco

pero usted se ha parado a pensar cuáles son las políticas de vivienda que tienen en las comunidades autónomas que ustedes lideran se ha parado a pensar y a hacer una simple comparación intente analizar

busque una sola comunidad autónoma liderada por el partido popular en la que haya una ley de vivienda ya no le digo un derecho subjetivo a tener esa vivienda

ninguna usted dice que aquí hay personas que

y eso es faltar a la verdad porque todas esas personas que llegan a esa situación desde el departamento de vivienda se les ofrece una alternativa

muy pocas personas salvo en casos muy muy muy extremos que se queden desamparadas

quiere que le diga cuál es la alternativa la calle la calle esa es su alternativa

le voy a pedir que por respeto a esta cámara y sobre todo por respeto a la ciudadanía se informe analice compare y como decía el anuncio si encuentra una comunidad liderada por el partido popular que tenga algo mejor de lo que tenemos aquí tráigalo

los instrumentos pero por favor no sea tan demagógica no no

desde su partido con los instrumentos internos que tiene y ahora que usted está liderando el partido popular de gipuzkoa en todos esos órganos internos que tienen en el partido popular

que tenemos en materia de vivienda en euskadi para que por lo menos los ciudadanos del resto de españa tengan algo a lo que agarrarse cuando se quedan en la calle gracias eskerrik asko

concluimos hoy este pleno con una propuesta que traemos con el

el protagonismo que realmente han tenido en la historia empecemos por reconocer que históricamente a las mujeres se les ha relegado socialmente

la participación en los diferentes acontecimientos históricos políticos y culturales

no es por tanto difícil de entender tampoco han tenido la oportunidad de pasar a la historia pero además han sido sometidas a una doble marginación cuando su contribución conquistada a base de valentía

ha sido ignorada y prácticamente borrada de la historia por eso nos parece de justicia reivindicar su papel en la historia visibilizando su contribución

hoy traemos a esta cámara una humilde pero simbólica propuesta para incrementar la presencia de las mujeres en los libros de texto y es que el contenido de los libros de texto tiene mucha más importancia de lo que parece a simple vista porque a través de ellos no solo transmitimos conocimientos transmitimos sobretodo valores y paradigmas modelos de pensamiento marcos que configuran

es verdad que nuestra legislación educativa aboga por la igualdad pero todavía

continúan reflejando los estereotipos de la sociedad actual y cuesta encontrar en ellos referentes femeninos un estudio importante sobre este tema

ana lópez navajas en la universidad de valencia y que puso de manifiesto

un siete coma seis por ciento nos parece escandaloso este porcentaje tan pequeño en algunas especialidades la mención era aún menor el cinco por ciento en matemáticas

la tesis determinó que había una exclusión sistemática de las mujeres en los contenidos

la falta de referencias femeninas a sus importantes y continuadas aportaciones culturales en todas las áreas seguramente si hubiéramos podido investigar más en el fondo de por qué estos datos

con que los propios redactores de los libros de texto no son mujeres y seguramente por esto

pero este hecho implica para los estudiantes el desconocimiento

y por tanto que les estamos transmitiendo un acervo cultural amputado y empobrecido al mismo tiempo que esta falta de reconocimiento cultural

implica para las mujeres una minusvaloración social inaceptable que las condiciona negativamente impidiendo su desarrollo individual en igualdad de condiciones las mujeres se convierten así en ciudadanos de segunda y los alumnos y alumnas salen de la eso con la creencia de que las mujeres no han hecho nada relevante y que son figuras marginales en la historia de la ciencia y la cultura todo ello pone al sistema educativo en cuestión

la transmisión de referentes culturales básicos y la educación en igualdad de oportunidades la tradición cultural de creación femenina como han fundamentado los numerosos estudios de mujeres en las últimas décadas abarca todas las áreas del saber y del hacer

sin embargo apenas se conoce se hace necesario hoy desde aquí destacar modelos como por ejemplo el de la donostiarra felisa martín la primera doctora en física de españa en mil novecientos veintiséis y la primera meteoróloga vasca que puede servir de inspiración para que las alumnas se orienten por los estudios stem ciencias tecnología ingeniería y matemáticas también debemos recordar hoy a la humanista maría de maeztu

en un libro de cuarto de la eso a la escritora bizenta mogel a la tonadillera

a la escritora maría mestayer de echagüe a maría goiri

a la corresponsal cecilia de guilarte nacida en tolosa a concepción andrés picado

conocida como conchita montenegro nacida en san sebastián en mil novecientos once a la periodista francisca de aculodi a la fotógrafa eulalia abaitua

a la soprano josefa cruz de gassier a la poetisa matilde orbegozo

conocida como txikita de anoeta son solo algunos nombres de mujeres que en un campo u otro sobresalieron y que están ausentes de los libros de texto

luego no es que no haya es que las hemos borrado es que las hemos ignorado y por tanto podemos hablar de historia robada o copiando el título del trabajo realizado por miren aintzane egiluz la historia ignorada una visión sobre el papel de las mujeres en la vida pública de hernani

hoy se trata de recuperar un poco esa historia y otorgarles a todas esas excelentes mujeres

pero sin sus aportaciones tampoco se puede entender la historia de la pintura de la música de la ciencia de la medicina o de la ópera como dice

la exclusión de las aportaciones de las mujeres a la historia supone una pérdida cultural importante y una falta de rigor por tanto

es una propuesta que va a favor de nuestros alumnos

que creemos de justicia con las mujeres causa que supongo que compartimos todos en esta cámara y con ese espíritu hemos propuesto una posible transacción a los partidos que sustentan al gobierno pero

su mejor oferta era reducir esta propuesta a siete palabras siete renunciar a la inclusión en el currículum y añadir tres puntos más de su cosecha es decir

por parte del rodillo si quieres un acuerdo debes renunciar a todos tus puntos de vista y aceptar los míos porque en todo caso se aprobará mi propuesta

integrar a la oposición como dijeron esto es aplicar el rodillo parlamentario porque quiero y porque puedo había

yo entiendo que la diferencia fundamental que nos ha separado ha sido la incorporación al currículum no entiendo por qué ustedes no quieren incorporar esto al currículum para nosotros es importante incorporarlo en el currículum por una razón porque si no se queda en agua de borrajas porque si no no se consigue nada porque si no no pasa de ser una mera declaración y estaríamos una vez más perdiendo el tiempo

pero tampoco lo estamos planteando en una exigencia de tiempo se puede llegar a un acuerdo de fechas de plazos de lo que sea

un poco de voluntad al respecto para que esto se plasme de verdad en algo concreto mire y su propuesta

pero nos parece que es insuficiente nos parece que se queda en nada nos parece que es una vez más

es una pena que en un tema tan blanco como este tan bien intencionado y tan constructivo

de cuál es su actitud real por otra parte tenemos

que insiste en montar una ponencia al respecto

nos parecen básicamente una enorme pérdida de tiempo y de dinero

no es que no sepamos lo que hay que hacer por lo tanto la ponencia para qué si lo que hay que hacer es relativamente sencillo es relativamente fácil lo que hay que hacer es hacerlo

o dos años en una ponencia escuchando aportaciones de unos y de otros para al final llegar a ninguna conclusión

y es verdad que estamos otra vez en una posición bienintencionada

empeñados en que estas cosas avancen y que estas cosas se conviertan en iniciativas reales que se haga algo al respecto y qué podemos hacer realmente para incorporar el papel de la mujer en los libros de texto pues incorporarlo

a través efectivamente del currículum con el tiempo que quieran en los plazos que quieran como se pueda como se deba pero

y nada más muchas gracias eskerrik asko

legebiltzarkideok bueno vaya por delante que esta iniciativa está ligada a la defensa que hace

que debe regir todo el sistema educativo desde la infancia hasta los estudios superiores apostando

y gratuita como garantía democrática para el conjunto de la población como digo desde mi grupo apostamos por una plena dotación económica y humana de nuestro sistema público de educación y abogamos por la incorporación de la perspectiva

en los contenidos pero también en las prácticas de los centros porque es un poco irónico que debatamos sobre la inclusión de más referentes

sin mostrar unanimidad en terminar con la segregación por sexos en los centros educativos porque no pueden entenderse como acciones desligadas unas de otras este es el resultado de creer que el compromiso con la igualdad puede hacerse de forma moderada o parcelada o siempre cuando no nos resulte incómodo compartimos el punto

pp ciudadanos porque compartimos también las principales conclusiones que se derivan del trabajo doctoral al que hacen referencia en la justificación

es que para empezar como en muchas otras cuestiones se haga un blanqueo y se excluya en todo momento hasta el propio lenguaje usado en la justificación de esta iniciativa que lo que está ausente del currículum

sino que la ausencia más grave es la del acervo cultural político de conocimiento

que sigue perpetuando una visión androcéntrica del mundo y lo hace a través del ámbito que juega un papel clave en la prevención y erradicación de desigualdades

es imprescindible tener conocimiento de la historia del feminismo

con ausencia de nuestras creadoras de nuestras científicas de nuestras políticas

el franquismo durante cuarenta años de dictadura nos borró todo eso desde luego hubo un momento en el siglo veinte en este país en el que las mujeres tenían una presencia que tiempo después hemos tenido que recuperar

de manera original y solito el franquismo el borrado de los aportes de las mujeres

nosotras a nivel estatal en el pacto de estado en materia de violencia de género defendíamos que tenía que haber medidas de igualdad y que no tenemos que ir

a todo el caldo de cultivo que hace que toda esa violencia salga es decir a la desigualdad es decir no solo a referentes de mujeres sino que tengamos también

no puede ser que cuando estudiamos el siglo diecinueve estudiamos el movimiento obrero el socialismo el marxismo y no la historia del feminismo

una teoría del pensamiento político cuando no se obvian otras y sí te enseñan por ejemplo qué es el capitalismo qué es el ecologismo

sino de una forma primero deliberada y luego inconsciente por la mayor parte de la población no podemos olvidar en nuestros libros a las que usted ha mencionado pero también a simone de beauvoir kate millet a angela davis

a clara campoamor a federica montseny y tantas otras es una pérdida para todas tenemos una tarea urgente a resolver con nuestra memoria feminista y con nuestra genealogía

porque las mujeres hemos estado participando y construyendo propuestas de futuro y de presente en todos los ámbitos de la vida

ligar esta iniciativa al aumento de referentes en un único espacio o contenido educativo pero sobre todo no entendemos que se quiera trasladar que es una cuestión de incluir solo más nombres femeninos sin entrar a valorar que no estamos hablando de una

sino de calidad esto supone porque esto supone obviar que hay que mirar también qué tipo de referencia son en los libros de texto si son principal o secundaria o si estamos únicamente

colectivo las que fueron inconformistas las incómodas las que aportaron a la revisión crítica del mundo en el que vivíamos las que transgredieron con su cuerpo y su sexualidad esas igual las vamos a dejar fuera nuevamente porque es necesario hablar de las once de basauri y su lucha por el derecho al aborto

de las maestras de las misiones pedagógicas o de las primeras jornadas feministas que se celebraron en democracia o el propio encuentro que tuvimos hace ya casi dos años en durango es necesario mencionar

a día de hoy el hilo de luchas feministas de aportaciones de construcciones feministas que hemos construido nosotras y no puedo acabar sin mencionar lo que ha ocurrido en la historia del arte

desde todos los ámbitos la literatura toda la expresión artística hay una brecha enorme que no se ha sabido solucionar porque se ha fijado un canon predominante desde la ausencia de las mujeres y también

que no estuviera dentro de ese canon si cogemos cualquier antología contemporánea vemos que de veinte nombres hay solo dos mujeres

de literatura la ausencia de mujeres es total y ahí podríamos pensar qué ocurre qué pasa

invisibilizadas en ese campo hay una clara mirada diferenciadora de género que comete el mayor de los agravios que es borrarnos que es borrar la memoria de muchísimas creadoras y empobrecernos como sociedad

en el momento en el que piensas que mujeres de la generación del noventa y siete

desde el momento en el que eso no entra en el examen no importa y aquí estamos hablando de la selectividad nada que no entre en un examen a día de hoy con el sistema educativo que tenemos durante la educación primaria o secundaria tiene relevancia dice un estudio de ana lópez navajas

que de cada cien nombres propios que se estudian en la enseñanza obligatoria

y tres de mujeres si nos acercamos a la edad contemporánea lejos de corregirse esa brecha se acrecienta todavía más inexplicablemente

hace poco tuvimos la ocasión de escuchar en la comisión de educación a las personas que venían de agora elkartea de jakin mina

en los exámenes de selectividad de filosofía porque parece que en la selectividad

algo está cambiando algo está cambiando y lo veíamos en la

pero tenemos que cambiarlo de base no solo con nombres

sí gracias presidenta señorías es una evidencia

del contenido que han estado en el que han estado casi ausentes en el relato

pasos para mejorar esta situación el ministerio de educación

que no tiene competencia en la elaboración de los libros de texto no obstante recomiendan el trabajo a las editoriales en la línea que recoge nuestra legislación educativa de fomento de la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres

acordado en el dos mil diecisiete ya indicaba la necesidad de incluir una referencia mayor de mujeres en los libros de historia el mayor estudio sobre la presencia de las mujeres en los materiales educativos

navajas de la universidad de valencia en la que analizó ciento quince manuales de tres editoriales y contó de media un siete coma cinco por ciento de apariciones de mujeres en todas las asignaturas de la eso

reciben un conocimiento histórico incompleto basado

masculinos y no a la totalidad de la población y no se trata de buscar la paridad

pero sí eliminar la infrarrepresentación existente a pesar de la mejora conseguida en los últimos años las editoriales aseguran que cada vez

y llevan desde mil novecientos noventa y seis teniendo en cuenta esta cuestión en la elaboración de los libros en materiales curriculares y orientaciones para centros

no se puede obligar aunque por supuesto han de cumplir con el currículo y todas las obligaciones legales hay muchas editoriales dispuestas a mejorar desde hace muchos cursos escolares y son conscientes de esta brecha y trabajan para conseguir

esto supone no solo incorporar referentes femeninos sino también garantizar un uso inclusivo del lenguaje

y evitar estereotipos mostrando ejemplos de participación igualitaria de las personas como referentes pero el problema fundamental para avanzar con mayor rapidez

y las editoriales del sector tienen a veces diferentes posiciones ideológicas que pueden ir por un sentido o por otro

unos libros u otros al igual que las administraciones han de velar las mujeres entren en esos currículos educativos y puedan facilitar a los centros unos criterios orientativos a la hora de elegir materiales didácticos

y de otras aquellas formas de discriminación ya que solo a través de un sistema educativo de calidad inclusivo e integrador se garantiza

de oportunidades haciendo efectiva la posibilidad de que cada alumno y alumna desarrolle al máximo sus potencialidades lograr el equilibrio entre los referentes masculinos y femeninos que se muestran en los libros de texto es una de las principales reivindicaciones de la coeducación y un paso importante para conseguirlo a juicio del grupo parlamentario socialistas vascos es fomentar la igualdad

en cualquier materia y a cualquier nivel este esfuerzo se está traduciendo en un enfoque más igualitario en los libros de texto y en las

para los estudiantes pudiendo y debiendo hacerlo también con modelos femeninos y también hay que poner en valor en este debate

a la que hemos hecho referencia cuando hemos debatido en el pleno de hoy en el punto tres

y tendido por eso no voy a entrar más en profundidad a hablar de esta estrategia no hemos conseguido

transaccional se ha intentado nosotros con respecto al grupo

que hacía incidencia en el tema del currículum no

en la línea establecida por la legislación actual en la que se flexibiliza que los centros puedan incorporar diferentes cuestiones

también intentado el acuerdo con el grupo eh bildu además ambos grupos hacíamos hincapié incidíamos en la necesidad

de mejorar la formación del profesorado en el contexto del plan de coeducación

a un acuerdo con lo que nos hemos

nuestra enmienda a la totalidad la enmienda firmada por el grupo nacionalistas vascos y el grupo

el parlamento vasco insta al gobierno vasco a contribuir a la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica con especial atención a estas

referentes vascas como uno de los pilares básicos de nuestro plan de coeducación

inspirar vocaciones y aspiraciones profesionales en el ámbito stem con especial atención a las alumnas nada más y muchas gracias

emango diot gonzález andreari para que no se quede cojo como decía usted

más concretamente la ley de igualdad en vigor recoge en su artículo veintinueve que la administración educativa

e integrará en el diseño y desarrollo curricular de todas las áreas de conocimiento y disciplinas de las diferentes etapas educativas los siguientes objetivos

construidos según los patrones socioculturales de conducta asignados a mujeres con el fin de garantizar tanto para las alumnas como para los alumnos posibilidades de desarrollo

también recoge la integración del saber de las mujeres y de su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad revisando y en su caso corrigiendo los contenidos que se imparten

zuzenketako bigarren puntuan jasotakoa gure ustetan estuki lotuta baitoa ya que en el año dos mil dieciocho el departamento de educación del gobierno vasco presentó la estrategia steam en euskadi diseñada con el apoyo

científico técnica en todas las etapas educativas y además persigue inspirar vocaciones y aspiraciones profesionales

en las alumnas y promocionar una cultura científica entre la sociedad honen inguruan jada gaurko hirugarren puntuan luze

a santo de qué saca el tema del rodillo nosotros lo hemos intentado con usted y con el resto de grupos y con quién no lo hemos intentado desde el primer momento me parece

al compartir cuál era la intención del grupo que sostiene al gobierno en este caso porque en el qué estamos de acuerdo todas y todos el problema es el cómo y el qué

vigente del año dos mil cinco y también a nuestro segundo plan de coeducación y al cómo berriro ere noa hezkuntza legeak ahalbidetzen duen ereduari

usted ha hecho una intervención muy interesante sin ninguna duda en la que lo que ha hecho es elevar el tiro por encima de mi propuesta es decir en nuestra propuesta ya lo he dicho antes es bastante humilde solo pretende en realidad

referentes femeninos en los libros de texto no abrir un debate teórico sobre

que no me parece que no sea interesante pero que creo que procede en otro momento quizá quiero decir

claro por ejemplo pues también podíamos haber pensado y podíamos hablar y es un tema que está pendiente el que podamos incorporar también referentes lgtbi que faltan completamente en los libros de texto y que ya no solamente es una cuestión de justicia es una cuestión también de futuro porque hay muchos niños y muchas niñas al respecto

ningún referente pero es que esta no era la cuestión que la cuestión era

usted creo que confunde a las mujeres con el feminismo son cosas distintas es decir yo comparto

en todos los sentidos y me parece que se debe incluir

en ese concepto y que todo el mundo lo conozca a fondo y sepa lo que significa

pero repito esto es otra cosa estábamos hablando aquí de otra cuestión que era de algo más sencillo que era simplemente de una cuestión de justicia que era incluir referentes de mujeres no bueno señor arrese gracias por poner fotos a las caras de muchas de las mujeres que yo he mencionado hay muchas más podríamos haber traído todos muchísimas más hemos coincidido además en muchos nombres

casi infinito no dice usted que se le hace raro que traigamos nosotros esta ponencia pero eso porque no nos conoce o mejor dicho porque nos conoce desde una perspectiva

por ejemplo en fin el patrimonio de la defensa de ciertas causas como esta no es ni de ustedes ni de nadie la causa de las mujeres

que el mejor favor que le podemos hacer es no patrimonializarlo por parte de nadie

que nuestra propuesta es genérica pues qué le tengo que decir de la suya aunque me he encontrado con la sorpresa de que cuando faltaba un minuto para empezar esta intervención

por cierto una transacción muy diferente al anterior en la que claro ya me ha llamado la atención que en sus intervenciones anteriores ninguno hablase de la famosa ponencia

sino a ellos y efectivamente en la nueva transacción ha desaparecido de la famosa ponencia y han hecho una transacción que me parece interesante yo le he leído la verdad es que un poco rápido porque no me ha dado tiempo

es decir con lo cual no veo por ahí ningún problema y estamos de acuerdo

estamos de acuerdo en que hay que insistir en el tema de la formación del profesorado claro que sí y no nos parece mal ese enfoque tampoco es decir pero lo que ocurre es que no creemos que la causa del problema es decir la causa de que haya mujeres ausentes en los libros de texto sea

a ver son cosas distintas es decir que haga falta hacerlo no es que eso sea la causa del problema en consecuencia sería insuficientes si nos quedáramos solamente en esto por eso nos sigue pareciendo que la inclusión en el currículum repito con los plazos con los calendarios que ustedes consideren oportuno hay que hacerlo es más estamos convencidos de que en esto

pero pasará un poquito de tiempo y quedará como que es una iniciativa no importa eh lo que importa es que se haga lo que importa es que se haga

que se pueda aportar en fin creo que hoy perdemos todos una oportunidad la oportunidad de

ante la opinión pública cogidos de la mano para un acuerdo en un tema en el que estamos en el fondo de acuerdo

es decir estamos todos de acuerdo en que se incorporen referentes mujeres en los libros de texto y la verdad es que todo lo demás son ganas de
buscarnos entre nosotros diferencias artificiales es una pena que hayamos perdido esta oportunidad nada más muchas gracias eskerrik asko gil jauna

haya traído esta iniciativa y que hayamos tenido la oportunidad de debatir sobre la misma aunque no hayamos podido llegar

enmienda transaccional porque las mujeres todos estamos de acuerdo que han hecho muchas cosas que son referentes en muchas cosas pero no se acaba de plasmar en los libros de texto

han realizado y estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho también el señor gil señora gonzález que no rodríguez gonzález esta

trataba de conseguir una mayor presencia en los libros de texto de las mujeres y no de que se meta o se introduzca

que también podemos estar de acuerdo en que se enseñe pero no era el fondo de esta iniciativa el fondo de esta iniciativa era que se ponga en valor todo el trabajo y todo el conocimiento

y que aparezcan en los libros de texto muchas mujeres que son referentes y que deben de ser referentes y que se incluyan en los libros de texto

tengan conocimiento de ello nosotros hemos hecho un esfuerzo como ha dicho

hemos hecho un esfuerzo en llegar a un entendimiento e intentar conseguir una enmienda transaccional

el último segundo nos hemos encontrado con la enmienda transaccional que nos ha llegado a los escaños y que hemos tenido conocimiento de ella en ese momento pero bueno

a la totalidad que hemos firmado y presentado el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista vasco como he indicado en mi primera intervención nada más y muchas gracias

ez genuela el marco jurídico creemos que ya está establecido previamente por la ley de igualdad por el plan de coeducación y con posterioridad también por la nueva ley de educación aprobada recientemente y entendemos que estamos actuando en concordancia con la misma y que es adecuado

yo creo que usted ha dado con la clave que efectivamente la formación del profesorado

es fundamental muchísimo más que incorporar la materia en el currículum esto es

al profesorado para que ellos sean capaces de ver esa necesidad de incorporar a mujeres referentes sino que también la perspectiva de género en general de manera transversal en toda su labor docente la clave es la formación y además lo venimos comentando en todos los trabajos

que estamos teniendo comparecencias y demás por ejemplo en el ámbito de la modificación de la ley de igualdad todas las personas expertas nos están diciendo lo mismo que la formación es la clave